el principal deterioro observado entre dos mil dieciséis y dos mil dieciocho se asocia al incremento de la pobreza en las familias

en este grupo el impacto de pobreza real ya aumentaba entre dos mil catorce y dos mil dieciséis para intensificarse la línea alcista en el periodo dos mil dieciséis dos mil dieciocho con una incidencia del quince por ciento

edo lan konkretuari ekingo diogu esta investigación nos habla también de la incidencia de la ausencia de bienestar que tienen el cuarenta y siete coma dos por ciento de las familias monomarentales sin ocupación estable

recogen un setenta y cuatro por ciento de los casos de pobreza real en dos mil dieciocho por encima del setenta y dos por ciento en dos mil dieciséis y del setenta y tres coma cuatro por ciento en bi mila hamabi podemos hablar de un general en las familias con hijos e hijas a cargo y especialmente en las monoparentales vuelvo a repetir necesitamos más datos para ponernos

más solas que nunca vosotras salir luego a hablar de que tenemos ayudas y tenemos propuestas para ellas

estudios sobre las familias monoparentales perceptoras de renta mínima de este año y no querría

que habla sobre la pobreza y exclusión social desde la perspectiva de género en la comunidad autónoma

donde en las conclusiones se dice específicamente que la pobreza y la exclusión social en la que se encuentran las mujeres ha aumentado en la comunidad autónoma entre los años dos mil ocho y dos mil quince y se ha agravado

en la situación de aquellas mujeres y familias monoparentales que ya se encontraban en situaciones de pobreza y exclusión tenemos que seguir esperando a que españa legisle tenemos que seguir esperando un diagnóstico

aipatzen zuen bere ikerlanean en más solas que nunca

prekarietate eta ezegonkortasun egoerak nagusitzen direla guraso bakarreko etxeetan y seguimos y seguimos y podemos seguir dando de todo lo que se está recogiendo ya en las investigaciones todos estos últimos años eskuartean dugun lan berrienean inkestatutako emakumeek adierazi zuten

como por ejemplo la noticia del año pasado en el que se especifica el ararteko especifica sobre la denegación de etxebide a la ayuda que pidió una mujer que se solicitó información sobre su expediente y constató

monoparental cuando lo era

sin embargo el ararteko considera inadecuado que cada departamento u órgano que forme parte de la administración pública vasca mantenga un criterio particular

monoparental además define que la situación de monoparentalidad no debe establecerse únicamente en función de hijos e hijas que es lo que se está haciendo hoy en día sino de la constatación económica por cierto señora garrido explíquele a su compañera de bancada que creo que le está explicando en estos momentos que ayer votamos una propuesta a favor que presentó su grupo en la que se pedía que las familias monoparentales tuvieran ayudas específicas

que tanto elkarrekin podemos como euskal herria bildu votamos a favor pero que hoy explíquele que al no haber definición no habrá

que pueda adecuarse a esa ayuda porque en la comunidad autónoma vasca todavía no tenemos ese criterio unificado beraz

hoy debatimos una propuesta para abordar la urgente necesidad de la familia formadas por una sola persona adulta de referencia

lo debatimos en primera instancia reconociendo sus necesidades específicas

acceder a unos niveles de bienestar y ejercicio de derecho que de algún modo apoyen desde la equidad a familias que parten de una evidente situación de desventaja de partidas respecto de su capacidad de acceso disfrute y ejercicio de los derechos

monocromática compuesta por madre y padre y eso hace que las políticas públicas se adapten a este imaginario colectivo y dejen desprotegidas a todas las que se salen de lo estadísticamente más frecuente

y no no voy a volver a repetirme pero sí que quiero incidir en la idea de que es indispensable que consensuemos un concepto porque sin eso podemos estar

haciendo políticas sin cimientos consensuando políticas con ideas diferentes sobre quién las va a recibir y protagonizar y eso condiciona mucho el éxito o el fracaso de las mismas con las familias monomarentales o monoparentales pasa lo mismo si no partimos de una definición común vamos a hacer las mejores políticas yo no lo creo

y por otro porque es indispensable hacerlo y es el hecho de que las familias monoparentales están encabezadas mayoritariamente por mujeres concretamente en el conjunto del estado un ochenta por ciento

es por ello que la perspectiva de género y espero que en eso no tengamos desacuerdo la transversalización de una mirada feminista es indispensable para abordar

si atendemos por ejemplo a la raíz etimológica del término del latín parens pariente que proviene de parís y que a su vez probablemente de par que puede significar igual

y hay quienes décimos que el lenguaje es político y lo que no se nombra no existe

monomarentales estamos de acuerdo en esto yo no lo creo son o deberían ser consideradas o beneficiadas igual que las familias numerosas hay partidarias de que sí se haga hay

como una forma urgente de acceder a beneficios y consideraciones porque hasta ahora la tipología de familia monoparental está absolutamente olvidada pero hay muchas que dicen

no lo sé deberíamos acaso diferenciar la situación y la condición de monoparentalidad estamos de acuerdo en esto no lo sé tampoco lo creo

la acción número cuarenta y dos que dice consensuar una definición operativa de las situaciones de monoparentalidad

para la determinación de las situaciones de monoparentalidad que pueda ser aplicada a todas las actuaciones del gobierno curiosamente esta acción ni está calendarizada

por lo tanto no sabemos cuándo la podemos esperar pero es indispensable por eso creemos que es bueno que hoy seamos capaces de abordar en esta cámara este debate

es que todo apunta a que hoy no va a salir más de lo que ya hay para elkarrekin podemos dialogar y nombrar es fundamental pero siempre siempre

nosotras creemos que es fundamental definir y nombrar pero escuchando a quienes saben nosotras en esta cámara somos una mera herramienta y además de consensuar un término aquí

que proteja a las familias monomarentales de la realidad precaria que viven y abordar todo esto para nosotras supone abordar una adaptación de los recursos y servicios

a los que ahora las familias no acceden en condiciones de igualdad no están siendo reconocidas o lo son en mucha menor medida que otras familias o con un impacto que se separa de lo que necesitan en su día a día y es urgente

unos datos demoledores el diecinueve por ciento de las personas en situación de ausencia de bienestar

el nueve por ciento de las que están en pobreza real son mujeres frente al cuatro por ciento

de la población que en euskadi se encuentra en situación de pobreza real un quince por ciento son familias monoparentales y más de un treinta de las que se encuentran en ausencia de bienestar pero es que si miramos el dato concreto de las familias monoparentales menores de cuarenta y cinco años sin ocupación estable

son la mayor parte de las familias monoparentales casi el sesenta por ciento están en situación de pobreza y más del ochenta en ausencia de bienestar eta honek

catorce veces pero las nombra solo pura y exclusivamente para adaptar ayudas económicas cuestión que conocemos

y no siempre funciona porque de facto está dejando fuera dos cuestiones que para nuestro grupo son fundamentales y creemos que también son fundamentales para las familias monomarentales

en condiciones a un catálogo de recursos y servicios desde la equidad es decir poniendo a cada cual lo que necesita para que ejerza derechos en condiciones de igualdad la segunda la que tiene que ver con la participación porque esto no puede convertirse en un todo para ella sin ella abordar esta definición sin contar

normativa hay que hacerlo con ellas hay que hacerlo con el movimiento

y a quien tiene las necesidades y ya está bien de dejarlo para luego se nos plantean a la hora de intentar alcanzar algún acuerdo algunas dificultades que para nuestra coalición no es sino un reflejo de la poca o nula voluntad que existe de dar pasos adelante

cuanto menos me quedo sorprendida sorprendida porque en elkarrekin podemos creemos firmemente en el autogobierno y sinceramente son para estas cosas para las que tenemos el autogobierno en euskadi existe una ley de familia que dentro del marco legislativo actual al igual que por ejemplo

podría contemplar una definición propia de lo que son familias monoparentales pero no solo existe un título específico por ejemplo que acredita la condición de familias monoparentales en cataluña en cantabria en valencia en aragón y en nafarroa

está incompleta y obsoleta pero por qué no dar pasos aquí si no hay nada que nos lo impida en segundo lugar se afirma con ligereza que no se ve la necesidad de un catálogo de servicios

y de nuevo me sorprendo porque creo que todas compartimos que las familias numerosas y las familias monomarentales tienen necesidades y características e incluso potencialidades y realidades

no se las puede ni debe homogeneizar porque estaremos ocultando una realidad y marchando con un piloto automático sobre una cuestión en la que muchas mujeres y sus hijas e hijos están como define save the children en su informe más solas que nunca

que no tenemos clara definida o consensuada será un diagnóstico más para la foto datos hay pero por qué no avanzar hacia políticas concretas aprovechando el turno de réplica señora garrido a mí también me gustaría que me explicase por qué ayer en el monográfico en la comisión de educación se lleva una propuesta que hoy no se trae aquí en definitiva nosotras creemos que seguir como hasta ahora pero que aparente que hacemos nos seguirá dejando peores datos en todos los baremos para estas mujeres

pero adelante con proposiciones o acuerdos para que nada cambie en los que no se escucha ni se habla con nadie nosotras seguiremos abiertas a acuerdos y a propuestas que mejoren de verdad

eskerrik asko señora etxebarrieta por la generosidad de haber tenido en cuenta los aportes de elkarrekin podemos a su propuesta

y no es tarde para actuar con coherencia y para actuar con cabeza votar a favor de esta proposición sería la mejor opción porque sinceramente

con no aceptar propuestas que no vengan de ustedes que con el sentido o no de que salga adelante un avance para las familias monoparentales besterik ez mila esker

dice la transacción suscrita entre el grupo

se emprenda un proceso de trabajo abierto a la participación de las entidades y asociaciones que defienden los intereses de los hogares monoparentales

de monoparentalidad que asegure un criterio de actuación homogéneo para toda la comunidad autónoma

el planteamiento yo realizaría una cuantas puntualizaciones

cuestiones alas que se hace referencia y cuando se dice que se tenga en cuenta la participación de algunas entidades de algunos sectores podíamos también ampliar

creo que tampoco viene mal hablar de un estudio previo y un análisis de la situación de las familias monoparentales en el país vasco que es lo que recoge

popular luego se habla de desarrollar modificaciones legislativas oportunas para el efectivo desarrollo de los derechos implícitos en la definición consensuada de monoparentalidad

realizar modificaciones legislativas pero nosotros hablamos de adoptar medidas

equiparándolos a los de las familias numerosas antes de la finalización de la legislatura

esta era también en la reivindicación básicamente que contenía

eh bildu y a nosotros desde luego nos parece necesario avanzar

monoparentales arbitrando medidas y ahora me voy a referir a atender las dificultades que estas familias tienen especialmente en el ámbito de la conciliación y en el ámbito de la vivienda pero no creo que sea oportuno hablar de equiparar dos realidades de familias

y las familias numerosas que nada tienen que ver en sus necesidades es más cuando hablamos de las necesidades de las familias monoparentales en algunas

o de lo que se está avanzando con el colectivo específico de familias numerosas por lo tanto creo que

o de equiparación entre los dos colectivos es algo que no es exacto y que no se corresponde con la realidad de los dos colectivos a los que nos estamos refiriendo efectivamente en españa hay dos millónes de hogares de familias monoparentales y el ochenta por ciento

donde el progenitor es la mujer y

como todos sabemos parens en latín no solo se refiere tanto al padre como a la madre sino que procede etimológicamente del verbo parere es decir

el término familia monoparental es

o los hijos efectivamente hay que caminar hacia la adopción de medidas específicas y que den respuesta a las múltiples necesidades pero como he dicho sobre todo estas necesidades y las problemáticas específicas que presentan este tipo de familias

leer y hemos podido estudiar y que tenemos a nuestro alcance

en el ámbito de la conciliación y en el ámbito de la vivienda cinco comunidades autónomas como se ha dicho aquí

monoparentales algunas a través de leyes específicas pero no todo ha sido a través de leyes sino también vía decreto como se ha dicho aquí son cataluña valencia aragón navarra cantabria y también madrid está

a la plasmación en un texto normativo de medidas concretas para ayudar y para suplir las deficiencias que pueda presentar este colectivo por lo tanto creo que nuestra iniciativa o nuestra enmienda de a la totalidad presentada es más exacta que la enmienda

hablamos claramente de que se haga un diagnóstico de la situación de las familias monoparentales en euskadi con sus necesidades y una vez que hayamos tenido ese

necesarias para su situación creemos que es un texto mucho más exacto

de transacción que nos habla claramente de equiparar la realidad de las familias numerosas con las familias monoparentales creemos también que es más exacta que la enmienda de totalidad presentada por el partido nacionalista vasco que además se insta directamente al gobierno de españa a que se incorpore en la modificación de la ley cuarenta barra dos mil tres de dieciocho de noviembre de protección

del grupo popular yo tampoco creo que haya habido mucha aproximación en relación a intentar un acuerdo porque la intención de los dos grupos que han suscrito la enmienda de transacción al final el objetivo era incluir

en la fase digamos de realización de la definición del concepto a una serie de colectivos ya tasados que obviamente que nosotros entendemos que podrían incluirse en cualquier caso otros muchos colectivos

tal y como está redactado señora guanche se entiende así creo que son realidades distintas que cada una tiene sus necesidades en algunas cuestiones las medidas que se implementen serán similares en otras no por otra parte sí que tengo que señalar que en el último cuarto plan de familia sí se hace referencia a la realidad de las familias monoparentales

específicas y tanto es así que este grupo y teniendo en cuenta que una de las dificultades que acompañan a las familias monoparentales tienen que ver con el ámbito

a la hora de conciliar la vida personal la vida familiar y la vida laboral nosotros ya hemos propuesto en esas iniciativas que tanto les aburren que a la hora de regular las excedencias se tengan en cuenta las

tanto las excedencias por hijo a cargo como las excedencias por reducción de jornada

afortunadamente creo que también gracias al impulso y a la labor constante de este grupo de reivindicar medidas en este sentido ha habido pequeños avances por parte del gobierno por tanto creo que más allá de perdernos también en enunciados y en textos

a ningún sitio porque parece ser que no se va a lograr un acuerdo en esta cámara también hay que bajar al terreno con medidas concretas

metiendo más dinero intentando elevar las cuantías y los porcentajes de ayudas como digo por esa conciliación en el ámbito concreto de la reducción de jornada y por los hijos a cargo besterik gabe eskerrik asko

sí gracias presidenta hoy debatimos

situaciones de pobreza que puedan padecer las familias monomarentales según una encuesta elaborada por el

ha aumentado un cero coma tres por ciento pero las familias monoparentales están entre las que más aumentan en un año los hogares formados por uno o más hijos o hijas aumentaron un tres coma dos por ciento es un tipo de familia en aumento habiendo crecido desde el dos mil dieciséis

rozando los dos millónes de hogares aunque se llaman familias monoparentales podían llamarse monomarentales dado que el ochenta y dos coma siete por ciento de estos hogares están encabezados por mujeres de ahí el encabezamiento de la iniciativa

tiene un perfil joven y es menor de cuarenta y cinco años existiendo tres realidades diferentes mujeres separadas divorciadas y madres solteras

unánime del concepto de monoparentalidad a falta de una legislación estatal en la materia y existiendo una legislación solo en varias comunidades autónomas como los diferentes grupos parlamentarios estamos poniendo de acuerdo pero ni siquiera son iguales entre ellas también existen unas grandes diferencias entre los beneficios que pueden tener en unas comunidades autónomas

es que más de la mitad de estas familias están o pueden estar en riesgo de pobreza cifra que contrasta con el veintiocho coma uno por ciento en general del resto

puede estar desempleada y no contar con otro ingreso o sueldo adicional en el hogar

así como de pobreza infantil predominan en estos hogares aunque

ha estado reivindicando en los últimos años una mayor protección una equiparación de trato en derechos con las familias numerosas y mayores beneficios fiscales

es imprescindible el impulso de una legislación estatal de familias monoparentales el pionero fue la comunidad de cataluña

monoparentales equiparándolas en derecho a las familias numerosas siendo presidente de la generalitat el socialista josé montilla

se legisló concediendo a dichas familias monoparentales beneficios fiscales y se le dio acceso a diferentes servicios en el dos mil dieciséis

descuentos de trenes beneficios en el irpf en madrid en el dos mil diecisiete el grupo socialista presentó una iniciativa para reconocer

y deducciones que fue rechazada en marzo del dos mil dieciocho mi grupo parlamentario presentó en el congreso de los diputados una iniciativa para asimilar las familias monoparentales a las familias numerosas y se ha incluido en el programa de elecciones del partido socialista tanto en abril del dos mil diecinueve

de noviembre por tanto con esa equiparación nosotros como he señalado en las diferentes

de acuerdo entendemos que el concepto de monoparentalidad debe venir regulado sin embargo en una legislación estatal para que haya una igualdad en su definición y determinación de las situaciones de monoparentalidad siendo

autónomas esos derechos reconocidos que a lo mejor podrán ser mejorables pero que pactamos de un mínimo común igual

dentro de la ley de apoyo a la familia del dos mil ocho no se recoge una definición de familias monoparentales sin embargo en nuestra comunidad

específica no quiere decir que no hayamos estado haciendo cosas sí que se han estado haciendo cosas y políticas

a beneficiar a estas familias monoparentales

como son el acceso preferente a programas de empleo inserción socio laboral

dentro del plan director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte

en las ayudas económicas de conciliación de la vida laboral y familiar y reducción de jornada

las cuantías a las familias monoparentales y en el proyecto de reforma de la renta de garantía de ingresos se mejora el tratamiento a las unidades familiares

con menores de edad a su cargo y se establece un complemento específico para familias monoparentales por otro lado no vemos necesaria de un catálogo como se plantea dentro

original tenemos que seguir avanzando sin embargo en este camino

nuestra enmienda a la totalidad la enmienda que hemos firmado con el grupo nacionalista vasco los socialistas vascos donde el parlamento insta al gobierno español a que incorpore la modificación

a las familias monoparentales también

se insta al gobierno vasco a lograr un consenso para definición operativa de las situaciones de monoparentalidad

de estas situaciones para que puedan ser tenidas en cuenta en las actuaciones que desarrolla el gobierno vasco

de familias monoparentales en euskadi hemos intentado efectuar una transacción con el grupo popular no hemos no ha podido ser por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es defender nuestra enmienda

nacionalista vasco y el grupo socialista vasco nada más y muchas gracias

a las familias de euskadi al cual le he hecho mención tiene como su objetivo

la diversidad familiar y las relaciones intergeneracionales se marca como este objetivo número siete

de formas y vínculos familiares promover las relaciones intergeneracionales y reconocer la contribución de los abuelos y abuelas al cuidado de sus nietos y nietas

consensuar una definición operativa de las situaciones de monoparentalidad y promover un acuerdo de gobierno que fije los criterios necesarios para la determinación de todas las situaciones de monoparentalidad

que consideren de alguna forma esta situación y es que cabe decir en relación con las familias monoparentales que en la sociedad actual la familia nuclear tradicional va siendo cada vez menos

y hay cada vez más hogares pero son más pequeños de hecho

solo vive una persona y aunque el tipo de hogar más numeroso continúa siendo el de una pareja con hijos e hijas el que más creció el año pasado es el de los hogares monoparentales

evidenciando los cambios sociales y familiares que se están produciendo como decía las familias monoparentales siguen aumentando personas solteras que adoptan divorcios y o separaciones padres o madres que emplean métodos artificiales o naturales para tener hijos sin casarse

el ochenta y uno coma tres por ciento de los hogares monoparentales son en realidad monomarentales

no obstante el número de hogares encabezados por padres creció el año pasado más del doble un dieciséis

en dos de cada tres de estos hogares el progenitor convive con un solo hijo y en el caso de las madres el treinta y ocho coma cinco son viudas

un trece por ciento solteras y otro doce por ciento casadas errealitate honi erreparatuz zer egin dezakegu

que tengan cargas familiares directas las que se integren en una familia monomarental

en situaciones de especial vulnerabilidad la puesta en marcha de servicios para conciliar procesos de inserción sociolaboral con el cuidado de hijos e hijas con especiales dificultades de conciliación y la promoción de las medidas e índole jurídica y económica necesarias para mejorar las condiciones de las personas

como consecuencia entre otras causas de la viudedad o del impago de pensiones compensatorias y alimenticias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial o en los casos de nulidad matrimonial separación legal divorcio extinción de la pareja de hechos o procesos de filiación o de alimentos la casuística es muy variada

de promoción pública así como para dar respuesta a las necesidades de vivienda de colectivos como las familias numerosas o monoparentales las medidas

a las familias ya las ha mencionado la señora sánchez no las voy a repetir

la medida número treinta y cuatro en cuanto a la mejora el tratamiento de las unidades familiares con personas menores de edad a cargo en el marco del sistema vasco de garantía de ingresos por lo que se contempla

y todas estas medidas si se contemplan señora guanche por supuesto que están previstas y efectivamente hay que dotarlas de presupuesto

en quince días nos encontramos de acuerdo el debate presupuestario ese es el momento en cuanto a la medida número cuarenta y dos

monoparentalidad promoviendo un acuerdo de gobierno que fije los criterios necesarios para la determinación de las situaciones de monoparentalidad que pueda ser aplicada

no tenemos que seguir esperando tenemos que ser eficaces señora etxebarrieta ser capaces de dar respuestas

y no destinar todas las fuerzas y todos los recursos a modificaciones técnicas continuamente y a adecuaciones de las leyes

por eso los tiempos son importantes de ahí que nosotras entendemos que es mucho más beneficioso

lo que nos parece con su propuesta es que tenemos el parálisis por el análisis porque se

a traer aquí propuestas de que analicemos la situación cuando nos parece que tenemos datos

que nos dicen que tenemos que tomar ya medidas pero claro

sobre quién vamos a analizar la situación zeintzuk dira familia monoparental edo monomarental bezala

eta besteak kanpoan geratzen dira pobrezia arrisku larrienean daudenak hain zuzen la señora sánchez nos ha hablado sobre diferentes propuestas que se han hecho en comunidades autónomas que compartimos de hecho es que las hemos traído aquí como ejemplo

pues hoy van a rechazar una propuesta parecida a la que ustedes llevaron a madrid entonces bueno pues usted me explicará por qué aquí sí en el otro no pues igual

guanche el problema está en quién trae esa propuesta eta

eskerrik asko mahaiburu andrea vamos por partes señora

su propuesta es más concreta sí pero parte en nuestra consideración de unos cimientos de barro porque si no entendemos lo mismo no vamos a construir igual

que a veces es el menos común de los sentidos sorprendentemente ha tenido usted oportunidad de construir un acuerdo ha tenido usted oportunidad de aportar lo suyo y no ha querido igual no me ha escuchado pero cuando hablamos de equiparar en nuestra enmienda hablamos de que tengan acceso a recursos y servicios por eso pedimos

específica eso no es lo mismo que seguir o que comparar a unas familias con otras yo

considero que es lo honesto que tal vez la redacción podría haber sido más específica pero usted también sabe que cuando uno busca llegar a acuerdos entre todas a veces hay que dejar pelos en la gatera usted no ha querido aportar no ha querido moverse solo ha dicho que no lo ve y entonces

yo no tengo intención de reeditar el debate de la semana pasada y aquí con usted

teniendo usted tanta voluntad y su partido tremendo historial

yo insisto definición estatal es necesaria indispensable diría yo

es posible ahora mismo es posible pueden las familias monomarentales en euskadi seguir esperando de verdad bueno señora arrizabalaga usted demanda otro tono yo creo que he sido

y es lo que yo demando es que este tema urge de consensos e impulsos serios y compartidos y yo lo siento pero creo que es urgente sentarse a hablar y no solo de presupuestos y no solo entre nosotras creo que hay que escuchar

exige ir más allá y creo que es indispensable un previo que no solo diga el gobierno un previo

y que consensuemos porque en todo proceso de creación de consensos es indispensable contar con un lenguaje común y eso es lo único que hoy hemos venido desde la generosidad a defender aquí han nombrado tanto la señora sánchez como la señora arrizabalaga

actual y posiblemente futuro con esa terrible ley que tenemos ahora mismo en debate

para ayudar a las familias monoparentales y yo lo siento pero les niego la mayor a las dos y les niego la mayor

hace unos ocho o nueve años cuando lanbide

cuestión que se recortó hace como unos seis o siete años en el sistema de garantía de ingresos y que hoy ni está ni se le espera así que en el actual no estamos proveyendo a las familias monoparentales o monomarentales

para que puedan conciliar porque una de sus mayores necesidades es la conciliación y los servicios y recursos públicos no se la están prestando digan ustedes

y que tenemos ahora mismo en debate ayer hubo una experta abogada

asesora casos de renta de garantía de ingresos en al menos cuatro organizaciones que nos dijo claramente que a las familias monoparentales con esta reforma se les va a dejar peor de lo que están entonces por favor no vengan aquí a decir cosas que no son

no contiene perspectiva de género utiliza el lenguaje que está ampliamente superado y que lo ha reconocido hasta emakunde

no va a ayudar a ninguna familia ni a las familias estadísticamente

monomarentales no estamos de acuerdo en que todo se haga bien pero no obstante por coherencia y porque creemos que el abordaje de medidas para los derechos de las mujeres

abordarlos nos vamos a abstener ahora también tengo que decir que este es posiblemente el debate más absurdo que yo he tenido en esta cámara porque estamos usando los mismos argumentos para decir que estamos en desacuerdo y mientras tanto las familias

por no sentarse a abordar un consenso cuestión que yo sinceramente sigo sin entender y me gustaría que en su turno de réplica me lo explicase eskerrik asko guanche

perpleja porque parece que aquí no hay nada en relación a las familias

hay una definición claramente establecida en el diccionario de la real academia se adoptan medidas en relación a las familias monoparentales mire tanto es así que en la moción que debatimos hace una semana

pues este grupo ya planteó tener en cuenta la realidad de las familias monomarentales así como las numerosas como las que tienen algún miembro

o con alguna persona víctima de violencia de género tanto para las excedencias para atender el cuidado de cada hijo menor de tres años o también para la reducción de jornada en el caso de situaciones de especial necesidad y qué casualidad

quieren situarse a la vanguardia de la defensa de las familias monoparentales votaron en contra de estas dos iniciativas ustedes el grupo de eh bildu y el grupo podemos

para favorecer a los colectivos con mayores dificultades en mayor situación de vulnerabilidad para favorecer medidas de conciliación que es precisamente

y los informes o las conclusiones que tenemos en realidad a la situación de las familias monoparentales es donde radica el problema por lo tanto

nos hablan que se establezca un consenso con determinadas asociaciones que son las que ustedes entienden que tienen que ver

ciertos conceptos en esta cámara pero luego cuando traemos aquí medidas concretas como son estas que se votaron aquí la semana pasada ustedes votan que no o sea que

no deben de estar miren sí efectivamente

planteamos una medida concreta pero es que ustedes hoy no están planteando medidas concretas y para nada entra en contradicción lo mismo que no entro en contradicción las medidas concretas

con decir ayer en la comisión de educación en un plan concreto que el gobierno vasco incluya el concepto de monoparentalidad en el ámbito universitario a fin de que las personas en esta situación puedan beneficiarse de un trato más específico pues claro que sí

las familias monoparentales puedan tener ayudas

circunstancias claro que sí por eso la planteamos en dos párrafos la semana pasada que ustedes y ustedes votaron que no

y votaron que sí en el ámbito educativo pero es complementario el discurso que nosotros mantuvimos ayer con el que mantuvimos la semana pasada en esta misma

primera hablan de un proceso abierto participativo eso sí vuelvo a repetir con las entidades que ustedes consideran entidades cerradas por qué no amplían esas entidades

parte ya están definidos y que no partimos de cero son las entidades que ustedes consideran claro cuando nos hablan yo no sé lo que quieran decir ustedes yo me tengo que ceñir al texto que me han repartido

a las familias numerosas es decir que se equipare la realidad de las familias monoparentales a la realidad de las familias numerosas es lo que pone en su texto señora guanche por lo tanto yo como comprenderá no estoy de acuerdo con esta iniciativa no puedo estar de acuerdo cuando creo

de las familias numerosas y la realidad de las familias monoparentales es específica que tiene unas características también concretas y por lo tanto unas necesidades que atender en cada uno de los ámbitos por tanto iniciativas concretas las del partido popular las que ustedes la semana pasada votaron que no y ayer como el viento soplaba de otro lado parece que del sur seguimos con viento del sur pues parece que votaron ustedes

con debates que quieren plantear o que quieren hacer aquí planteamientos no sé si filosóficos o planteamientos yo no sé de qué tipo que además son ininteligibles porque es que no se entienden la redacción de su primer párrafo me la he tenido que leer cuatro veces me la he tenido leer cuatro veces porque es que no entiende lo que quieren decir

que asegure un criterio homogéneo yo me imagino que cuando

me imagino que a estas alturas otra cosa es que si se regula un ámbito concreto y una ley concreta o en un decreto concreto

y quede expresamente delimitado el ámbito de la aplicación de la ley eso es una cosa distinta que eso se hará a propósito de cada texto normativo pero no venga a decir aquí

de familia monoparental porque estamos adoptando medidas dirigidas a las familias monoparentales todos los días

han sido criticados como es el tema de la excedencia voluntaria a los progenitores no gestantes y que parece ser que además

la pasada semana en esta cámara pues se recogen medidas también en la linean que marcaba el partido popular a favor de las monoparentales o sea que ya sabemos a qué colectivo nos dirigimos

que como llegan ustedes pues vamos a tener que empezar a definir cada concepto porque no estaba definido yo creo que tampoco es eso aunque bueno yo

su ímpetu y sus ganas de hacer cosas pero creo que tampoco empezamos
por abajo sino que también aquí hay un recorrido en algunas materias que ustedes deberían de conocer besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

vamos a ver exista definición o no exista definición

se han venido haciendo cosas y se han venido realizando políticas dirigidas a ayudar a este colectivo nosotros le hemos pedido que apoye nuestra enmienda a la totalidad

dentro de la enmienda la equiparación a las familias numerosas que ustedes mismos piden pero lo hacemos de una determinada forma y es metiéndolo

del dos mil tres por eso nos gusta más nuestra enmienda

y la defendemos y no nos gusta su propuesta en los planes que se han venido aprobando en la legislatura en diferentes materias usted ha dicho que es que hay que hablar con todo el mundo si parece que no se habla con nadie si ustedes no lo ponen en una iniciativa pero vamos a ver si en todos los planes que se vienen realizando

se habla con los diferentes colectivos se han realizado planes consensuados en todo tipo de materias pero usted quiere darle la imagen

si no se pide directamente por ustedes dentro del escrito

porque cuando se hacen las cosas se habla con los distintos

dice que yo he hecho una relación que parece que quería hacer una relación de todas las cosas que ha hecho el pse pero a usted lo que le molesta es que usted no pueda hacer es relación porque ustedes no han hecho y nosotros sí

entonces ustedes están en madrid y ustedes allí podían haber impulsado también que se realizara

no lo han hecho por qué no lo han hecho y los señores de bildu exactamente igual no lo han hecho vienen aquí a hacer ver que gracias a ustedes

lo que hay detrás es que ustedes no han hecho nada en ninguna parte por eso le pedíamos que apoyara nuestra enmienda a la totalidad que apoyaran

dice que no le gusta que se hagan análisis pero si ustedes el grupo eh bildu y

de realización de informes si se han tirado tres años de la legislatura pidiendo que se hagan informes para todo

y qué han venido haciendo ustedes a lo largo de toda la legislatura nos han pedido informes de todo tipo de materias y hoy viene y dice no es que no me gusta hombre lo podrían haber pensado un poco antes

de todo tipo por otro lado en el caso de la renta de garantía de ingresos

es que evidentemente nosotros queremos que siga adelante y que se debata esta proposición de ley una proposición de ley de la renta de garantía de ingresos que

que estamos en el proceso de elaboración de enmiendas y si ustedes quieren y quieren meter enmiendas para enriquecer o cambiar determinados artículos están en este momento pero ustedes están en el rechazo por el rechazo en el no debate en absoluto de las enmiendas o de seguir en el proceso un año intentando llegar a un acuerdo más de un año no hemos podido llegar a un acuerdo estamos en el periodo de elaboración de enmiendas hagan las enmiendas las debatiremos y oye como en todos los debates que hay en esta cámara

pues del proyecto que entra es muy diferente al proyecto que sale porque a través de enmiendas se pueden cambiar muchas cosas así que si quieren ustedes meter cosas concretas
háganlo donde lo tienen que hacer que es ahí nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak

arrakala handiago agerian uzten duena decía también que hay que remontarse al año ochenta y seis para conocer unos datos de esta magnitud

de personas en este país al que todas representamos en esta cámara que tienen dificultades para afrontar los gastos que les permitan tener un nivel de vida adecuado

cifras que empeoran y mucho respecto al año dos mil dieciséis datos que empeoran

respecto al año dos mil dieciséis a pesar de que crece la economía y a pesar de que nos dedicamos a amortizar deuda datos que evidencian en definitiva

que lo pasa mal porque no puede comer carne o pescado una vez a la semana

porque no puede encender la calefacción en estos duros meses de invierno o que lo pasa mal simplemente porque tiene un empleo basura que no le permite llegar a final de mes y esas personas que a veces tratamos como simples números como porcentajes como cifras somos todas

podemos necesitar de políticas públicas potentes que nos protejan en un futuro eta datuetan sakondu beharrik ez dagoela uste dut

amaitzeko eta ez pobrezian dauden pertsonekin y nosotras como elkarrekin podemos lo hemos dicho por activa y por pasiva no valen las soluciones de siempre porque estos sistemas de protección tienen agujeros

a la que nos debemos y a la que tenemos que proteger entre todas gente que no accede a los sistemas de protección

que aún dentro del sistema no sale de la pobreza

un cincuenta y uno coma cinco por ciento del total de las personas que acceden

de las personas que acceden a los sistemas de protección social de euskadi siguen estando en situación

no podemos obviar que el riesgo de pobreza en euskadi ha incrementado un nueve por ciento en los dos últimos años o que el riesgo de pobreza grave

un cinco coma tres por ciento en los dos últimos años es que los datos no engañan y estos datos además son los datos del gobierno

para el presente y para el futuro y con esta moción que hoy presentamos pretendemos que se realice un abordaje de los mismos un abordaje preventivo

que debemos afrontar como país de nada sirve poner soluciones a posteriori es necesario crear mecanismos

el golpe siendo previsores siendo cuidadosos con las consecuencias que va a dejar la próxima crisis económica

porque en este aspecto también los datos hablan por sí mismos existe una revisión constante a la baja de las previsiones de crecimiento económico para euskadi

iba a crecer un dos coma tres por ciento el martes nos encontramos con el informe que publica bbva research quien en mayo

preveía un crecimiento para euskadi del tres coma uno por ciento y ahora baja esta previsión al uno coma siete por ciento es decir seis décimas por debajo

y uno coma cuatro puntos porcentuales menor a su previsión de mayo asimismo observamos también con preocupación

la caída de la demanda interna y del ahorro de las familias quienes buscan tener un colchón ante el desolador paisaje económico que dibujan los datos

por lo tanto bajan salarios o despiden a trabajadores y trabajadoras quienes a su vez no pueden seguir comprando productos y servicios ni ahorrar dinero para hacer frente a posibles imprevistos

que ponemos sobre la mesa una propuesta que es ambiciosa dentro del marco en el que estamos jugando una propuesta que tiene los elementos necesarios para construir

en primer lugar queremos que esta cámara muestre su preocupación compartida por los datos recogidos en la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año dos mil dieciocho

instamos a la creación de un plan de choque integral que aborde las consecuencias que este empeoramiento está trayendo sobre la ciudadanía porque si no lo hacemos

de una forma desastrosa para la mayoría social de este país este plan de choque como decía es integral y necesariamente tendría que llevar a cabo cuatro tipos de acciones en primer lugar acciones específicas para abordar la precariedad y las malas condiciones en el empleo así como la temporalidad y la brecha salarial y social

entre la euskadi de dos velocidades y porque no se puede hablar de igualdad sin reducir la precariedad en el empleo sin fomentar la conciliación

un reparto del empleo justo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado porque conocemos la alta tasa de

entre sectores fundamentalmente feminizados y también conocemos el riesgo que supone para nuestra economía

vamos a afrontar una nueva crisis económica en una situación muy diferente

donde casi triplicamos la tasa de desempleo de hace una década y donde los ahorros de las familias ni se les espera y es que sin buenas condiciones para las personas trabajadoras no hay avance posible sino solo el sufrimiento de una crisis económica

una vez más con las mismas personas con la mayoría social de este país en segundo lugar acciones específicas destinadas a abordar una adecuación de los sistemas de protección con el fin de que lleguen a todas las personas que lo necesitan y esto pasa

por el desarrollo del sistema de vivienda que plantea la ley de dos mil quince así como el desarrollo inmediato de la ley de servicios sociales que es cuidado del año dos mil ocho y aún once años después quedan pendientes de desarrollo

herramientas y el sistema de financiación pasa también por abordar la reforma de la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social

y desarrollo de herramientas para cubrir a las personas que actualmente dentro o fuera del sistema siguen estando en situación de pobreza

a avanzar no la reforma que ustedes tienen encima de la mesa porque sinceramente supone recortes

que una nueva crisis económica haría saltar por los aires todo el sistema de garantía de ingresos de euskadi y lo digo ya y de forma muy clara este sistema tiene sus años contados porque no más de sí y hace falta un cambio de paradigma tal y como lo están explorando diversos países a nivel mundial por poner un ejemplo o unos ejemplos

estados unidos canadá india o incluso con un presupuesto y competencias mucho menor a las que tiene el gobierno vasco ciudades como barcelona debemos explorar sistemas que garanticen y que profundicen en el derecho universal a la protección a las políticas inspiradas en el asistencialismo porque frente a quienes insisten en establecer límites a la protección

en términos de tiempos máximos de acceso o en medidas de contraprestación es importante señalar que acceder a una renta básica

no es una perversión social sino un derecho exigible creen ustedes que es defendible en pleno siglo veintiuno una concepción social que desatiende a gran parte de la población necesitada o que si la atiende lo hace percibiéndola como diferente

nosotras desde luego creemos que no y sinceramente y no es algo nuevo desde elkarrekin podemos consideramos que la única forma de arreglar esto que tenemos sobre la mesa es que retiren ustedes esta proposición de ley y que entre todas construyamos un marco

a nivel mundial junto a tantos otros países que he citado anteriormente como lo estuvimos a principios de los años noventa necesitamos construir un marco que nos permita crear

y sobre todo una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres y continúo este plan

como son las mujeres mayores de sesenta y cinco años las familias monoparentales y las familias

son los colectivos más afectados por la pobreza según esta encuesta y precisan urgentemente de un abordaje integral sin este abordaje integral no hay capacidad para hacer frente ni a una crisis económica ni a un reto demográfico como el que este país tiene

y por último acciones específicas orientadas a mejorar la capacidad de la juventud vasca para desarrollar sus proyectos de vida de calidad y en condiciones de autonomía todo ello como una propuesta de escudo social que permita que la ciudadanía esté preparada y que permita a quien ha perdido el colchón de apoyo

irremediablemente en la vulnerabilidad social y ya para acabar quería reiterarme en una cuestión que hemos repetido muchas veces

y los sindicatos que son expertos en esta materia señores y señoras del partido nacionalista vasco del partido socialista de euskadi ha quedado claro que no tienen ningún apoyo para sacar adelante la reforma creemos sinceramente que visto lo visto

que retiraran esa proposición de ley y que la próxima legislatura abordemos

que nos permitan obtener un consenso político de calado para fortalecer el sistema de protección social justo cuando más lo necesitamos

los últimos datos de la epa dicen claramente que el número de desempleados en el país vasco aumentó en cinco mil seiscientos personas en el primer trimestre el paro ha aumentado un seis coma cinco con respecto al trimestre anterior

coma cincuenta de la media nacional y que euskadi es la comunidad autónoma donde más ha subido el desempleo es la cuarta concretamente

lo que tiene que ver con las bajadas de las previsiones de crecimiento económico ya tenemos

de la ralentización de nuestra economía una bajada del consumo

se quiere reafirmar en mantener que la mejor política social es el empleo politika sozial hoberena alderdi popularrarentzat enplegua da

por otra parte también creemos firmemente que si la mejor política social es el empleo por otra parte también hay que generar

un escenario que sea favorecedor de la generación de empleo también y viendo el excedente del dinero que ha tenido el gobierno vasco en los dos últimos años hemos considerado también importante presentar

del impuesto de la renta de las personas físicas pero con propuestas concretas y devolver el dinero al bolsillo de los ciudadanos después de los esfuerzos que se hicieron en momento

me estoy refiriendo a dos acuerdos concretos uno que tiene que ver con un plan de choque para los parados de larga

el diez de octubre del dos mil diecinueve es decir hace poquito una iniciativa en la que se hablaba de promover un nuevo plan de choque permanente para

desempleadas de larga duración hablamos de un protocolo específico hablábamos

en colaboración con las agencias de desarrollo y el conjunto del actual sistema de orientación hablábamos también de lanbide hablábamos también de garantizar de los planes de empleo

hablábamos también de potenciar herramientas para la certificación de conocimientos cualificados adquiridos por personas trabajadoras mediante experiencia laboral es decir hablábamos de un plan de choque que contara con los recursos presupuestarios necesarios para su correcta implementación

ampliable según la demanda y después de realizar una evaluación por lo tanto también hablábamos de que lanbide debería realizar una monitorización continúa del plan

en esta iniciativa y en este acuerdo concreto digo iniciativa que se debatió en esta cámara y en este acuerdo concreto ya se hablaba de un plan concreto de choque para los parados de larga duración por eso nos ha parecido importante recuperar este acuerdo por otra parte también se

respecto a la situación de los jóvenes que es otro de los colectivos realmente salpicados por el empleo muchos tienen dificultad para encontrar un empleo y otros

están en situación de precariedad laboral por no decir aquellos que buscan más allá de euskadi en el resto de españa en otros entornos que tienen más oportunidades como puede ser madrid barcelona ahora obviamente menos pero provincias también o regiones próximas como pueden ser zaragoza o como pueden ser valencia o también como se van

países de la unión europea en ese sentido también

situación de los jóvenes a la hora de emanciparse hablábamos de la reducción de la brecha salarial de las personas de menores de treinta años

de la vivienda y de actuaciones concretas en el ámbito de la vivienda y de un plan operativo como decía

por lo tanto que entiendo que estas cuestiones han sido debatidas recientemente esta última también el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve y por lo tanto hemos

que viendo que son acuerdos aprobados además por unanimidad en esta cámara instar de nuevo al gobierno vasco a que cumpla el contenido

que su iniciativa más bien obedecía a dar respuesta a estas realidades y las respuestas a estas realidades pues estaba recogida como digo en estos acuerdos que hemos traído hoy cámara para instar al gobierno nuevamente a su cumplimiento por otra parte había un colectivo que con estas dos iniciativas se nos quedaba descolgado y sí vimos que también se había aprobado otra iniciativa en relación a colectivos con especiales dificultades de empleabilidad como son las mujeres y en ese sentido

de ampliar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las mujeres

un tema recurrente en este parlamento por parte de este grupo parlamentario las cosas están como están todos sabemos

pero sí que creemos oportuno que al margen de las modificaciones legislativas pertinentes y la demandada modificación de la ley para la garantía de

sí que es cierto que también al margen de como digo de las concretas modificaciones legislativas y que

en el parlamento nos parece oportuno seguir insistiendo con esta cuestión y seguir volviendo a instar al gobierno vasco

que las hay las estamos viendo además en numerosos informes que se remiten a esta cámara y por otra parte en algo también que

a convertir lanbide en un servicio eficaz para conseguir un empleo

pues está claro que actualmente no funciona de forma eficaz para la consecución de un empleo y por dar respuesta al resto de las

la nuestra es más exacta porque hace referencia a acuerdos concretos aborda

jóvenes y mujeres por otra parte hace una referencia al sistema de protección al funcionamiento de lanbide

aspectos y la enmienda del partido nacionalista vasco creo que es un tanto

obviamente consideramos más adecuada nuestra enmienda de totalidad que es la que votaremos y que en principio

que consideramos que es la pertinente para abordar esta materia besterik gabe eskerrik asko

a debatir una moción consecuencia de interpelación planteada por el grupo elkarrekin podemos referente a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca pudimos escuchar en el pleno del once de octubre la intervención de la señora

en la línea de intervenciones anteriores en las que se presenta una imagen apocalíptica de las condiciones de vida de la ciudadanía vasca acabamos de escuchar también una intervención similar en el punto anterior y ahora hemos escuchado al señor bollain y lo que digo es que

apocalipsis ni mucho menos tampoco estamos en un oasis

tiene acostumbrados a sus discursos apocalípticos otras comunidades autónomas nos envidian por el sistema de garantía de ingresos que tenemos por nuestra ley de vivienda o por nuestro sistema de servicios sociales por supuesto que hay que seguir trabajando en mejorar

en nuestra comunidad autónoma pero no compartimos su imagen catastrofista de la situación actual y porque queremos seguir mejorando hemos iniciado

de garantía de ingresos y para la inclusión mediante la proposición de ley hay que seguir dando pasos para luchar

y social en el desarrollo de nuestro sistema de servicios sociales nosotros estamos de acuerdo lo hemos hecho en los últimos años y así el gobierno vasco aprobó la estrategia y el plan operativo para reducir la brecha salarial en euskadi en el consejo de gobierno del veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho

euskadi se sitúe en los cinco países de europa con menos brecha salarial y se recogían tres retos la de eliminar la discriminación salarial reducir la segregación ocupacional y profundizar en una educación

la igualdad y además se destinan recursos económicos para ello

y el dos mil veinte y el contenido de la estrategia y el plan operativo

se desarrollará en coordinación entre los diferentes departamentos del gobierno vasco afectados un grupo interinstitucional y la mesa de diálogo social de euskadi el foro sobre brecha salarial en euskadi el ejecutivo vasco tienen en su acuerdo de gobierno de la

legislatura el compromiso de impulsar la igualdad efectiva y por ello se presentó este documento ya que la brecha salarial es uno de los factores que reproduce esa desigualdad entre hombres y mujeres

importante eliminarlo y para combatir esa desigualdad salarial que es un problema complejo y multidimensional se presentó este plan

que no se ha hecho nada que no hay ningún plan en esta materia ya hemos debatido en varias ocasiones también

que desde la inspección de trabajo el departamento de trabajo y justicia venido realizando desde el principio del año dos mil diecisiete en la lucha

irregular recientemente puse de manifiesto

de esa campaña donde se han conseguido conversiones de contratos temporales en indefinidos y contratos a tiempo parcial en jornadas completas

entre enero de dos mil diecisiete y primeros de octubre de dos mil diecinueve se habían revisado cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y uno contratos y convertidos

contratos y además se inició en julio del dos mil dieciocho se puso en marcha por el gobierno de pedro sánchez a nivel estatal

no voy a entrar a explicar este plan porque ya lo he hecho en otras ocasiones el incremento en los resultados de la inspección de trabajo se ha conseguido con un pequeño incremento de inspectores en la plantilla porque

utilizando mejor la herramienta de cruce de datos big data para detectar posibles incumplimientos en las contrataciones a las empresas

el despliegue y desarrollo del sistema vasco de servicios sociales cumpliendo el plan estratégico de servicios sociales con el fin de consolidar el sistema vasco de servicios sociales

es por ello por lo que consideramos más correcta nuestra enmienda a la totalidad la enmienda que hemos presentado el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista vasco

y el desarrollo del sistema vasco de servicios

abordando y dando cumplimiento en colaboración con el resto de instituciones vascas a lo previsto en el plan estratégico de servicios sociales al objeto de consolidar

servicios sociales y también el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que desarrolle las políticas de inclusión social desde una perspectiva

vasco de inclusión y también el parlamento vasco con la finalidad de implementar la mejora del sistema de garantía

parlamentaria de la proposición de ley sobre garantía de ingresos en su iniciativa el grupo proponente elkarrekin podemos

se aborde la precariedad laboral la temporalidad y la brecha salarial pero es que este plan operativo sobre brecha salarial ya existe

en mi intervención y respecto a la reforma de la renta de garantía de ingresos ya está presentada sería positivo como he dicho

que se presenten las enmiendas una vez concluidas las comparecencias en la comisión de empleo y políticas sociales y podamos debatir y enriquecer el texto que está presentado en estos momentos para eso mi grupo parlamentario

también quieren incluir acciones de choque para mujeres mayores de sesenta y cinco años familias monoparentales y familias con hijos acabamos de debatir sobre familias

ustedes piden un plan de choque donde mezclan unas materias con otras

que están incluidas en diferentes planes y además a su vez

ya estamos viendo que empiezan a pedir ustedes en iniciativas recientes que aparte de este plan de choque que parece en esta iniciativa que es más global van a empezar a pedir ahora sus planes de choque porque lo vemos que en una iniciativa recientemente presentada también por ustedes van a pedir o han pedido un plan de choque contra la precariedad laboral en el sector entonces vamos a empezar ahora aparte de pedir el plan de choque global empezaremos con sus planes de choque no y entonces iremos troceando luego este plan de choque en sus planes de choque

esta forma de funcionar no nos parece la más correcta el grupo eh bildu no ha presentado ninguna enmienda y por tanto

la iniciativa original ya lo escucharemos en la intervención del grupo eh bildu al que todavía no hemos podido escuchar por no haber presentado esa enmienda

con el grupo popular mediante una enmienda transaccional no ha podido ser tampoco en este caso por lo que nosotros considerábamos le propusimos cambiar la propuesta de las iniciativas que ponían nos parecía más correcto hacer referencia a la

considerábamos que la moción a la que veinticinco barra dos mil diecinueve en cuanto a jóvenes ya se estaba haciendo

en la gestión en la renta de garantía de ingresos pero bueno esas medidas para subsanarlas ya están recogidos en la proposición de ley que está presentada

es entrar en la tramitación de la misma aportando todos lo que queramos aportar por eso vamos a apoyar nuestra enmienda a la totalidad la enmienda presentada por el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista vasco nada más

ante todo una línea de estabilización desde el dos mil catorce situándose en el seis coma uno baina pobrezia arriskuak gora egiten du erkidego honetan

nunca ha habido tantas personas en situación de riesgo de pobreza grave en euskadi datu positiboak daudela aipatu du urrutia jaunak eta guk ez ditugu

sube cinco puntos los hogares que no pueden hacer frente a un gasto imprevisto gora

cae el bienestar casi completo y aumenta el bienestar con riesgo la incertidumbre gana enteros

margen para la duda y que reflejan de manera cruda las consecuencias de un empleo con salarios bajos

en diez años la pobreza real ha pasado de concentrarse en el treinta y cuatro por ciento de los hogares encabezados por una mujer a hacerlo en el cincuenta coma seis de ellos ya hemos hablado de eso

arope pero también los datos indican que hay un repunte al alza de los indicadores de desigualdad y hay un repunte al alza del indicador gini que rompe con la tendencia que ha habido hasta ahora de reducción de desigualdad eta

ez du esan nahi que tampoco ni que haya que negar las fortalezas es verdad que ocupamos

una muy buena posición en el contexto estatal con salvedades y que en esa mirada

con algunos matices pues también estamos bien posicionados

de la existencia de indicadores y tendencias preocupantes no se puede caer en el conformismo y en la autocomplacencia

que me entresaque los datos de una encuesta que permitan salir mejor en la foto

con el estado ni con europa aunque entiendo que es importante

de una sailburu espero capacidad para ver las nuevas realidades que nos reflejan esos datos espero capacidad de entender y empatizar con las experiencias vitales

ambiciosos que se traduzcan en un nuevo impulso que permita superar inercias y recuperar el liderazgo y la iniciativa política mediante la puesta en marcha de políticas públicas de calado que ofrezca estabilidad protección y oportunidades a las personas para el desarrollo de sus proyectos de vida

prospectiva de adaptación y de anticipación eso y espero capacidad también de tejer acuerdos y complicidades para poner en marcha esas políticas porque esto es lo que este pueblo necesita para hacer frente a los retos que tenemos por delante bigarren bueltan

no pensemos tampoco que vamos a coincidir en las soluciones en este sentido

que ustedes tienen una pequeña obsesión con la empleabilidad como si esta fuera la panacea para todo pero yo le digo de verdad que un empleo de ochocientos euros al mes por trabajar remuneradamente cuarenta horas a la semana

o una remuneración indigna por lo menos creo que la empleabilidad por la empleabilidad no nos lleva a nada y nosotras vamos más para allá y queremos

y aquí probablemente pues no coincidamos tanto buscamos empleos de calidad empleo sostenible y también un reparto del empleo justo

auguran una destrucción de empleo neta la subsistencia de las personas señora garrido no va a poder estar ligada en el futuro ni al empleo ni a la activación de las mismas porque es un vínculo que se ha roto ya desde hace tiempo

en cualquier caso señora garrido la mejor política social será la mejor política social luego estarán las políticas de empleo en segundo lugar decía la señora sánchez

una imagen apocalíptica y decía el señor urrutia

que miramos los indicadores por separado le podría sacar las once diapositivas que sacó

pero la pregunta que se hizo en ese pleno fue qué van a hacer con los datos de la epds

los ha negado en esta tribuna hoy pero

he dado muy poquitos datos hoy he dicho

que tenemos gente que no accede a los sistemas de protección social son sesenta mil personas lo dice la epds no lo digo yo

tenemos personas que aún dentro del sistema no sale de la pobreza

más de la mitad de las personas que están dentro del sistema un cincuenta y uno coma cinco por ciento de las personas siguen estando en riesgo de pobreza o exclusión social una vez el sistema actúa y luego he dicho

el riesgo de pobreza en euskadi según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales

ha incrementado en un nueve por ciento en los dos últimos años y que el riesgo de pobreza grave ha incrementado un cinco coma tres por ciento los datos están aquí

pero es que si vemos la evolución es aún más preocupante

justo antes de la crisis vemos cómo los datos de personas en riesgo de pobreza en euskadi ha incrementado un veinte coma dos por ciento

grave de dos mil ocho a dos mil dieciocho ha incrementado un sesenta y cuatro coma nueve por ciento datos del gobierno vasco no me los estoy inventando y en último lugar

ah sí que esto no es una moción contra el gobierno esto es una moción para avanzar

para crear un escudo social ante una crisis que va a llegar más pronto que tarde que lo dicen los indicadores del gobierno vasco que baja sus previsiones de crecimiento a la baja trimestre tras trimestre

y lo que queremos es bueno este sistema

y tenemos que explorar tenemos que ser valientes para explorar lo que están haciendo diversos países a nivel europeo a nivel mundial un cambio de paradigma decía antes finlandia holanda escocia francia estados unidos canadá ciudades como barcelona explorar sistemas que garanticen y profundicen

inspiradas en el asistencialismo construir un marco que nos sirva para estar a la cabeza a nivel mundial como lo estuvimos a principios de los años noventa

y con valentía estaremos al lado pero no para repetir lo mismo que está haciéndose hasta ahora y que vemos que no está funcionando que los índices de pobreza

arriba y no hacen nada para hacer esto

para que la próxima crisis no afecte una vez más a la mayoría social a los sectores más vulnerables como pasó en dos mil ocho eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

dela pero lo que aquí me preocupa y a este grupo le preocupa la visión de falta de autocrítica de este gobierno del gobierno vasco creemos que este gobierno sigue instalado en la autocomplacencia y que los datos desde luego llaman al optimismo yo creo que hicimos un

del empleo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de los ciudadanos vascos hicimos

señor alfonso alonso hizo un repaso exhaustivo de la situación del país vasco

de alarma y como ante estos signos de alarma este gobierno claramente está mirando hacia otro lado creemos que es un signo de alarma evidente

donde más ha caído el desempleo ahí son cuatro comunidades autónomas en donde está euskadi

están ahí y son importantes y sobre todo son

comunidad autónoma que eminentemente ha sido una comunidad emprendedora por no hablar también de cómo está la tasa de emprendedores

en ese pleno no hace mucho tiempo hace poco más de un mes que también donde más empleo se ha creado el año pasado es en el sector público lo cual también es un signo preocupante en una comunidad autónoma emprendedora

empleo empleo empleo pero creemos que sin duda es la mejor política social es la política que permite oportunidades

creía pensar que este era el objetivo pero ya veo que según voy conociendo más los discursos de algunas formaciones políticas pues quizás algunos

o preferirían que las personas se cronificaran en determinadas situaciones y por ejemplo en el sistema de protección no saliesen de la situación del sistema de protección yo creo que

ciudadanía y a las personas hay que darles una oportunidad y lo que tienen que hacer los gobiernos y en este caso por eso tenemos que tirar de orejas en esta cuestión a este gobierno

herramientas específicas para ello competencias porque eso sí que es ejercicio del autogobierno ejercer las competencias en ámbitos concretos

y tenemos por ejemplo lanbide y lanbide no funciona bien lanbide no es una referencia para aquellas personas que buscan un empleo en la comunidad autónoma del país vasco lo sabe usted lo sabemos nosotros y creo que lo sabemos todos en esta cámara por lo tanto yo creo que obviamente

y servicios que tenían que estar al favor de la ciudadanía vasca y

claramente para criticar y poner de manifiesto

que este grupo habla de forma sistemática que es la pérdida de talento que tenemos en euskadi es que los jóvenes se nos van los jóvenes no ven atractivo quedarse en euskadi

conocer mundo en la medida de las posibilidades ir a otras universidades pero es que no vuelven no vuelven

hay ciudades de españa que son muchísimo más atractivas y ya no solo madrid

que es bastante importante y bastante significativa claro también

de desarrollos o de impulso a determinadas

del decreto de centros residenciales y cómo ese decreto no se ha hecho bien es decir el desarrollo en el ámbito de los servicios sociales ha llegado tarde y ha llegado mal

las medidas son claramente insuficientes y con el último decreto que esta cámara ha instado a que se corrija por establecer una discriminación en el ámbito de las

o por qué no hablar del déficit del problema que tenemos estructural con la baja natalidad y el índice de envejecimiento de la población que tenemos que hace que tengamos

cuando tenemos un déficit en el sistema de pensiones el año pasado en cuatro mil millónes de euros eso va para los que reclaman

lo podríamos hacer y también nos preocupa en el ámbito de la familia por ejemplo el último dato

y por no hablar y porque es un tema muy extenso pero sí me gustaría dar una pincelada al sistema de protección tenemos un sistema de protección que tiene muchos fallos
garrido anderea desde luego no es un sistema justo no están los que tienen que estar y no hay una buena gestión de las ayudas prevista

y desde luego lanbide es un servicio absolutamente ineficaz que no está ni a favor y no sirve para la empleabilidad

a los ciudadanos que viven en euskadi creo que de eso se tiene que ser consciente el gobierno vasco debería serlo eskerrik asko garrido

señor bollain nosotros sí que creemos que ustedes hacen me da igual llamarle un relato

de las políticas que se están realizando en estos momentos los datos están ahí y todos los ponemos sobre la mesa y que hay que seguir haciendo políticas para mejorar por supuesto pero en ello estamos absolutamente todos

los índices de pobreza dentro de nuestra comunidad autónoma se han paliado más que en otras comunidades autónomas gracias a nuestro sistema de garantía de ingresos eso efectivamente lo han reconocido todos los expertos y todos los que han pasado por esta cámara pero creemos que podemos mejorarlo y en ello estamos en este momento

para conseguir mejores resultados le he hablado del plan operativo de la lucha contra la brecha salarial

de las campañas que se están realizando en la lucha contra el fraude laboral desde la inspección de trabajo ustedes qué es lo que hacen pues si tenemos un plan de brecha salarial

como si no existiera hay que hacer otro plan distinto no han hecho ni referencia a la existencia del plan operativo existente

dicen ustedes no me gusta quiero otra si tenemos un plan en marcha sobre brecha salarial qué es lo que dicen ustedes no me gusta quiero otro hombre o quiero que me lo troceen a partir de ahora en trocitos más pequeños

de diferentes tipos de materias a nosotros eso no nos parece la mejor

planes mantenerlos en el tiempo aplicarlos para conseguir los resultados que se pretenden conseguir con ese plan

estar proponiendo ahora donde existe un plan ahora quiero que me lo cambien mañana y no le dejo que

continuamente o troceando continuamente y eso para nosotros no es efectivo por eso vamos a poyar nuestra enmienda

la reforma de la ley de garantía de ingresos en clave de avance

estamos a la espera de sus aportaciones realmente me gustaría

cuáles exponen ustedes como claves de avance y no creo que para eso haya que esperar a la próxima legislatura

esta proposición de ley tendrá el recorrido que tenga no sé ni me atrevo a hacer apuestas puede que cero

son las propuestas para hacerlo en clave de avance señora garrido autocomplacencia no autocomplacencia no es que tenemos unos mantras establecidos ya de autocomplacencia autocomplacencia ninguna

en mi intervención tres puntos sobre los que hay que incidir y los que la encuesta de pobreza

incidir en ellos gestión de deficiencias

hay una propuesta malísima deficiente insuficiente

hasta el momento ni están ni parece que se les espera gran cosa

izaten ditugun que esto no es una moción contra el gobierno

si lo fuera tampoco nos impresionaría demasiado quiere decir que y que

a la cabeza a principios de los años noventa pues sí pero

creo que los que pusimos a la cabeza esto fuimos básicamente básicamente nunca me atribuyo todo el mérito como tampoco me atribuyo nunca toda la culpa creo que estábamos los mismos que hoy proponemos algo

alarmistamente se cataloga de insuficiente

bai y bukatzeko el cambio de paradigma que en algunos países están haciendo nosotros no estamos cerrados

a ningún tipo de reflexión tampoco con respecto a lo que se está haciendo en estos países pero le repito seguimos

gracias señora presidenta buenos días a todos mis primeras palabras en esta cámara en una iniciativa relacionada

como no podía ser de otra manera tienen que ser de apoyo y reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de apoyo y reconocimiento

por ello desde el grupo popular queremos mostrar nuestra más firme condena a los actos violentos protagonizados en los últimos días por elementos radicales en cataluña

y las pérdidas económicas que están padeciendo queremos recordar especialmente a los agentes que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones

de las libertades de todos los catalanes recordemos que doscientos ochenta y ocho agentes de los distintos cuerpos policiales han sido heridos uno de ellos un policía nacional en estado muy grave como digo nuestro apoyo solidaridad y desearles una pronta recuperación y queremos denunciar la apertura de expedientes

indignidad también queremos aprovechar para apoyar la resolución aprobada por eurocop confederación europea de sindicatos de policía

y por los sindicatos de los mossos de escuadra denunciando la violencia contra la policía y exigiendo el respeto del estado del derecho y la vuelta a la normalidad de cataluña por eso hoy yo llevo este lazo que

distribuido por eurocop y que simboliza el apoyo a la aplicación de la ley saludar y dar

mis más sinceras gracias por asistir a los representantes de los dos sindicatos mayoritarios de la ertzaintza

y que su iniciativa esta iniciativa es su iniciativa porque precisamente surgió de una queja que erne trasladó al departamento y que remitió también a los grupos y también de las denuncias que han realizado al respecto de esta cuestión en la promoción veintiocho ha descendido el número de personas han sido un total cuatro mil setecientos cincuenta personas interesadas en ingresar en el cuerpo y entre las presentadas no se han encontrado candidatos suficientemente preparados para cubrir las setecientos plazas que se ofertaban así casi cincuenta plazas han sobrado porque finalmente solo seiscientos cincuenta y uno personas

hay sesenta que en este momento optan o están optando también a una plaza en la policía municipal y que si

van a ser menos de seiscientos los alumnos que van a tener frente como décimos a una oferta de setecientos en el año noventa y tres recordemos se presentaron nueve mil cincuenta personas hace cinco años cinco mil setecientos cincuenta y seis anteriores han tenido más personas y recordemos hemos vivido momentos en los que la ertzaintza estaba perseguida por eta bien

agentes o que finalmente cumplan los requisitos físicos psicotécnicos y de personalidad que exige la academia de arkaute

va disminuyendo tendríamos que saber cuáles son los criterios que se están utilizando para que como décimos

señalaba la consejera a una pregunta que le hicimos sobre esta cuestión que les preocupaba que la selección fuese la adecuada

y que la formación fuese la adecuada la mejor formación a nosotros también nosotros estamos de acuerdo con ello y queremos la mejor formación por ello consideramos que cuanto más atractivo sea el ser ertzaina cuanto más atractivo sea el periodo de formación el ejercicio de la profesión

y las posibilidades de una adecuada selección aumentarán lógicamente la plantilla de la ertzaintza ronda en este momento los siete mil doscientos agentes recordemos que

necesaria para cubrir la necesidades de policía de nuestra comunidad autónoma bien pues en este momento son ochocientos menos de los presuntamente necesitados

del dos mil diecinueve las jubilaciones rondaron los trescientos en los próximos

si a esta cifra unimos las más de cincuenta bajas anuales que se producen por fallecimientos incapacidades laborales y renuncias voluntarias puede suceder perfectamente

estoy convencida de que el partido nacionalista vasco su representante no va a perder la ocasión para recordar los problemas que hubo con el gobierno central a la hora de sacar las promociones pero no sé en este momento con el apoyo a sánchez y tan aplaudido pues dónde está el problema pero bien

completa es absolutamente necesaria porque en este momento no hay personal suficiente

y tráfico con continuos cambios de turno de trabajo con llamamientos a trabajar en días libres con un aumento de las cargas de trabajo como señalan desde instancias sindicales y nosotros compartimos

directamente vinculada a la percepción que la sociedad vasca tiene de la criminalidad y la eficiencia con que nuestra policía se enfrenta a ella

que se ha impuesto lo hemos dicho en muchas ocasiones se basa más en las estadísticas que en la eficacia y eso aleja

decirle a un ciudadano que tiene que esperar muchísimo para poner una denuncia o que vuelva al día siguiente o que se la haga él desde luego no es eficacia por eso tenemos que preguntarnos es atractivo en este momento

las condiciones laborales más allá de las remuneraciones son adecuadas claro porque cuando a un ciudadano le tenemos tres horas esperando

evidentemente como hemos dicho al principio en esta promoción la promoción veintiocho se ofertaban setecientos plazas de las cuales solo se han podido cubrir seiscientos cincuenta y uno que son los alumnos que han empezado en arkaute pero cabe preguntarse qué va a suceder

si las condiciones en las que tienen que ejercer su labor unido

porque tal y como explicábamos en la justificación de nuestra proposición no de ley los aspirantes

no van a pernoctar ya en la academia de policía autónoma vasca porque para la realización del curso de formación de carácter obligatorio y eliminatorio el régimen ya no va a ser de internado como era hasta ahora únicamente recibir el servicio de comida la razón nos la dio la consejera las necesidades de formación en este momento no solamente porque estamos ante una promoción numerosa sino también porque hay formación de policías locales y otro tipo de formación

por su parte supone un aumento de los ingresos de la academia no nos olvidemos pero eso hace que se reduzca el espacio disponible en la academia y por lo tanto los futuros agentes como décimos

lo cual suponía que se ahorraban el alojamiento durante el periodo de formación no tenían que pagar ni el desayuno y que ahora en este momento todo eso lo van a tener que pagar porque únicamente se les paga la comida y todo eso

euros mensuales como décimos antes

es que la alimentación la tenían pagada por lo tanto ahora nos encontramos con una modificación sustancial en las condiciones en las que están en la academia y esa modificación sustancial pues no se ha acompañado de otro tipo de modificaciones

dicha modificación además de suponer un agravio comparativo con las promociones que no ha sido compensada porque como décimos no se ha producido un aumento de las retribuciones también es un agravio comparativo con por ejemplo los policías locales que están

el sueldo que reciben los agentes que ya están en la calle como décimos la atribución económica mensual no ha variado

sí que ha variado las condiciones por lo tanto qué es lo que hay que hacer no vamos a hacer nada vamos a permitir

los alumnos que están ahora no les llegue con quinientos ochenta y cinco euros que se tengan que pagar los viajes que se tengan que pagar el alquiler si quieren

a alguien por ejemplo de irún tiene que venir todos los días

y si se queda a dormir en vitoria cómo con quinientos ochenta y cinco euros

del alquiler pero y si tienen familias y si tienen gastos que hacer

que abandonan sus trabajos no solamente desde que ingresan en arkaute en muchas ocasiones los abandonan previamente precisamente para formarse para estar capacitados para luego aprobar en la oposición porque no nos olvidemos que para estar en arkaute previamente han tenido que pasar una serie de pruebas pruebas teóricas pruebas físicas pruebas psicotécnicas

han abandonado sus trabajos y luego cuando ingresan cuando ya consiguen aprobar

euros mensuales de verdad esto hace atractivo el acceso

no es más atractivo en estos momentos ser policía local en euskadi esto supone

es que no cobran ni la renta de garantía de ingresos no llegan las cifras

la audiencia nacional creando jurisprudencia ha dicho que lo que se abone un trabajador no puede ser inferior a novecientos euros mensuales pues aquí ya vemos cómo se aplica esto el pnv se mostró en su día a favor de la subida del salario mínimo

eso sí a los aspirantes a la ertzaintza no les abonan ni esa cantidad recuerdo quinientos ochenta y cinco euros y como he dicho antes esto hay que contrastarlo pues con lo que reciben los aspirantes de la policía local y por poner ejemplos ayuntamientos como bilbao donostia durango eibar bergara tolosa irun etcétera

mientras están haciendo su periodo de formación perciben el sueldo básico que recibe un agente

habrá que ver en qué condiciones desempeña su trabajo y también en dónde las cuestiones de cercanía por lo tanto

en la academia de arkaute aspirantes a ertzainas y aspirantes a policías locales

y ustedes pretenden que en las siguientes promociones a la ertzaintza

plazas pues que se apunte masivamente

los jóvenes vascos esto es fomentar el empleo de los jóvenes vascos pues bien el artículo veintiséis del estatuto básico del empleado público establece que las administraciones establecerán las condiciones laborales de los funcionarios en práctica que como mínimo se corresponderán en sueldo

a ingresar dicha normativa de carácter básico fija la retribución mínima que podrá en su caso aumentarse a través de la negociación

servicio establece que el departamento podrá establecer las condiciones específicas para el abono de indemnizaciones no de ayudas de indemnizaciones

del personal atendiendo a las características de los cursos convocados tal y como señalábamos en la iniciativa creemos que estamos absolutamente en este supuesto porque el curso

y el número de desplazamientos a llevar a cabo a la academia es muy elevado por lo tanto ante toda esta situación y ante esta normativa de aplicación qué es lo que solicitamos

instamos al departamento de seguridad del gobierno vasco a que previa negociación con los sindicatos es decir que previa negociación en la mesa ciento tres regule las indemnizaciones por gastos de desplazamiento a la academia vasca de policía y emergencias a abonar a los funcionarios en prácticas

a los alumnos de esta veintiocho promoción que repito que sus condiciones han sido

para cubrir el coste que le supone trasladarse a la academia todos los días en segundo lugar instamos al departamento de seguridad del gobierno vasco a que

ciento tres incremente las retribuciones a percibir por los funcionarios en prácticas de la veintiocho promoción durante el curso de formación en la academia vasca de policía y emergencias y pasen a cobrar lo percibido como retribuciones básicas y complementarias de los agentes de la escala básica y que estos pagos se hagan efectivo desde el día

creemos que es una cuestión de intentar evitar los agravios comparativos con promociones anteriores y con otras policías que en este momento están estudiando

y solicitamos el apoyo de todos los grupos para esta iniciativa muchas gracias eskerrik asko llanos

señora llanos me tiene usted acostumbrada pero aun así me ha sorprendido esta declaración de amor esta especie de mezcla de publirreportaje semiperformance que hace usted que entiendo que tiene que ver con los tiempos

por la cual usted se pasa los cinco primeros minutos de su intervención hablando de todo menos de la iniciativa que hoy nos ha presentado y de las cosas que ha dicho

acontecido estos días en cataluña y yo solo quería añadir a lo que usted ha dicho que hay que dar solidaridad y apoyo a todas las personas que han

de alguna violencia en esos hechos y en esa línea y no entrando más en el barro

somos conscientes de que existe una situación concreta que entendíamos que era la que usted venía hoy a explicar en la academia de policía autónoma vasca en arkaute en lo que respecta

que tienen estas personas en la formación que son lo que entendemos que había que debatir en esta cámara

de eliminar las habitaciones para ampliar el espacio dedicado a las aulas para la formación

no van a poder dormir en las instalaciones de arkaute para realizar esta formación y el régimen

de internado y solo recibirán el servicio de comida

estamos de acuerdo porque como ya hemos manifestado muchas veces el modelo de seguridad que nosotras promovemos y promulgamos se asienta

completa integral y normalizada es decir que las personas aspirantes puedan recibir toda la formación necesaria en las diferentes áreas y materias y

de sus vidas que lo hagan evidentemente en espacios amplios y con el material necesario y que las personas aspirantes no pierdan el contacto con la realidad y el día a día además de tener en cuenta la conciliación con la vida personal de cada aspirante creemos que estas medidas son buenos mimbres para una ertzaintza transparente preparada consciente y conocedora de su propio

y formada ante nuevas realidades existentes que vulneran los derechos humanos pero como todas sabemos señora llanos

el espíritu recogido por la quinta modificación de la ley de policía de este pasado junio que se aprobó con los votos de los partidos que sostienen al gobierno y con el apoyo de su grupo parlamentario

nosotras desde nuestro grupo parlamentario ya señalamos las carencias e incongruencias de esta ley que no responde a la necesidad de un cambio hacia un modelo de seguridad humana esta nueva situación concreta

a tener según usted que viajar todos los días o bien pernoctar en vitoria con los gastos que eso conlleva

mensuales que reciben es verdad que algunos sindicatos entienden que para sufragar la propia formación

y los propios gastos de desplazamiento y en algunos casos el alquiler del piso nosotras comprendemos que en anteriores convocatorias

sí había pernoctación por lo tanto estos gastos no eran existentes ha habido una modificación que no ha sido compensada

los gastos de desplazamientos esta modificación de las propias condiciones laborales ha sido tomada de forma unilateral sin negociación sin diálogo sin consenso con los agentes

y entendemos que no es una situación de condiciones laborales dignas y en base a la modificación de ley que se aprobó en julio las nuevas personas que acceden al curso de acceso a la ertzaintza cobrarán como

que la promoción veintiocho por haberse convocado antes de la aprobación de la modificación de ley será retribuida en base

nosotras desde elkarrekin podemos siempre hemos defendido los derechos laborales y las condiciones de trabajo dignas para todas las personas que trabajan en la administración pública sin embargo la iniciativa del grupo popular nos parece

la propuesta de la señora llanos es cortoplacista se centra solo en la veintiocho promoción y no brinda vías para construir soluciones estables y sostenibles para la promoción actual y para las futuras promociones es parcial porque solo expone y propone una solución

tal y como sí hace nuestra enmienda que en noviembre a la vuelta de la esquina habrá cerca de trescientos personas aspirantes a policías locales para las que también hay que brindar

por eso presentamos una enmienda a la totalidad que abordará el problema y solución desde una perspectiva más general y garantista no solo a una parte de las posibles afectadas sino a todas por eso en nuestra enmienda

que brinde condiciones laborales y retributivas dignas así como que facilite todos los elementos temarios y materiales necesarios para una formación adecuada a los aspirantes funcionarios en prácticas de la veintiocho promoción de la ertzaintza

para lo cual evidentemente habrá que dialogar y negociar

sindicales sectoriales así que a todas luces nuestra iniciativa es más completa e inclusiva por ello

señora llanos de esta defensa que usted hace del salario mínimo interprofesional del fomento al empleo de los jóvenes vascos y esperemos que esta sea la línea en todos los sectores y en todos los ámbitos no solo en este eskerrik asko

presidenta señorías en el asunto que hoy nos ocupa es cierto que han sido modificadas las circunstancias en las que los aspirantes a funcionarios de la ertzaintza

en la academia de arkaute y también es cierto que hay una demanda una reivindicación que está razonada

para atender a ese periodo de formación los medios materiales a aquellas personas que tienen que dedicarse a la formación y que

y además con la posibilidad si no superan todas las pruebas si no hacen una formación optima

es en las que se produce este debate que ya tiene algún tiempo porque ciertamente la academia de arkaute durante

a un colectivo de aspirantes que

ertzainas y también es cierto que gozaba de unas instalaciones que permitían

y lo que conlleva el alojamiento en cuanto a la cena y al desayuno esas circunstancias han cambiado se ha explicado en esta cámara por qué han cambiado fundamentalmente por necesidades formativas por el aumento de la demanda que se hace para esa formación desde distintos cuerpos de la policía y también por la evolución de la propia formación a los aspirantes esta realidad nos lleva a algunas conclusiones la primera conclusión es que

la atención a quienes se están formando es una actuación ajustada a las obligaciones al derecho a lo que está

procedimiento de compensación por ese periodo formativo es decir no estamos ante un problema de legalidad en todo caso estamos ante un problema sobrevenido de modificación de circunstancias en las cuales se quiere algún tipo de sensibilidad de aproximación

poder paliar o mejorar la situación de la formación en cuanto a sus retribuciones

es un dineral para poder atender ese periodo de formación es evidente que es una cantidad justita que como digo va acorde a las obligaciones legales pero hay consideraciones de carácter económico

que yo creo que también es razonable atender por eso nosotros hemos presentado una enmienda en la que digamos que hay una aproximación

y que forma parte también de la preocupación de los grupos de esta cámara se habla en esa enmienda de la posibilidad de

ayudar mediante la subvención al transporte por no poder hacer

por intentar paliar el coste de lo que pueda significar el no residir aquí y por tanto el tener que hacer los viajes

a la academia y también se habla del desarrollo reglamentario de la ley de policía de la quinta modificación que recientemente se planteó para que ese desarrollo se hable de las retribuciones en relación

es decir hay una metodología que está establecida en la ley hay unas competencias que cada uno sabe cuáles son las suyas hay una legalidad pero hay también una aspiración de carácter social sindical económico político que me parece que es razonable los grupos que apoyamos al gobierno tenemos intención de atender como lo hemos señalado en nuestra enmienda de totalidad por lo tanto

que plantea la señora llanos y pudiendo incorporar ahí también las preocupaciones que plantea la señora garcía pues yo creo que esa enmienda es

para poder tratar y dar una respuesta adecuada a lo que hoy se plantea en esta cámara muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna

una vez escuchados a los y las portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra y a la espera de escuchar al portavoz de eh bildu

la primera que la misión fundamental de la academia vasca de policía y emergencias es la formación y además una formación de calidad

ematea en estas dos últimas legislaturas que son las que tengo conocimiento directo han sido varias las iniciativas aprobadas por esta cámara

en materias tan importantes y sensibles como la violencia de género los delitos informáticos los delitos medioambientales y los delitos económicos entre otros por lo tanto prioridad

y la previsión aprobada por unanimidad del consejo rector de la academia en diciembre de dos mil dieciocho del plan de actividades para este año dos mil diecinueve con más de doscientos cuarenta cursos

de que no hay sitio para su alojamiento con lo que es imposible el régimen de internado y tampoco hay sitio para aparcar es un problema ingestionable e insostenible el de los aparcamientos dicho esto ante esta situación el grupo popular con esta iniciativa plantea tres cuestiones primero regular las indemnizaciones por gastos de desplazamiento

segunda incrementar las retribuciones a percibir por dicho alumnado durante el curso de formación y en tercer lugar todo ello dicen previa negociación en la mesa ciento tres de ambas cuestiones planteatutako lehen kontua

desplazamendu gastuengatik kalte ordainak arautzea indemnización si miramos el concepto de indemnización es el resarcimiento

o perjuicio la pernocta no era un derecho la academia disponía de dormitorios concretamente trescientos ochenta camas para el uso del alumnado que iba a realizar cursos de duración superior a una jornada no siendo obligatoria la pernocta en ninguno de los cursos señora llanos hoy ha hecho aquí una serie de afirmaciones absolutas que no son ciertas no por ser absolutas no son ciertas

allí realmente todos los alumnos pernoctaban allí unos sí y otros no era un derecho que tenían a pernoctar

que es al que usted se refiere pero en la iniciativa y hoy creo que se lo han pasado mal no es el real decreto cuatrocientos sesenta y dos barra dos mil dos del veinticuatro de mayo el de la ertzaintza es cinco barra dos mil doce del diecisiete enero donde sí está ese artículo que menciona el veinte punto nueve que dice ese real decreto

uno que en su apartado tercero dice que el presente decreto

será la aplicación al personal funcionario de carrera de la ertzaintza

que hubiera superado la fase de formación del procedimiento de ingreso al cuerpo por lo tanto durante la fase de formación no les es de aplicación

sí cuando ya están en prácticas en una comisaría entonces tendrán

nuestra propuesta basándose en el plan de movilidad que usted conoce elaborada

es articular un programa de ayudas económicas al transporte colectivo del alumnado de los cursos de formación de ingreso apoyando así también una gestión más sostenible de la movilidad como se ha dicho la academia se tiene que ajustar a sus funciones y necesidades y en este caso ha sido necesario suprimir las zonas destinadas a alojamiento

y los espacios comunes se transforman en aulas de formación paralelamente y debido al problema de acceso a arkaute se ha trabajado el tema de la movilidad sostenible

y personal a formar para cambiar el tipo de movilidad y se ha elaborado el citado plan de movilidad sostenible antes del verano de este año se ha constituido una asociación mugiarkaute asociación sin ánimo de lucro cuyo objeto es facilitar el acceso a la academia vasca de policía y emergencias a quien lo desee actualmente hay ya fletados nueve autobuses seis desde gasteiz

se quiere que se utilice el transporte público incluso la academia también ha gestionado con la diputación foral de álava una parada en la academia para las líneas de agurain y araia transporte público

el capítulo cuarto de los presupuestos del dos mil diecinueve con una subvención nominativa para esta asociación por sesenta mil euros para el periodo de septiembre a diciembre

además esta asociación también puede presentar otras subvenciones como por ejemplo lb que en su caso

hay que tener en cuenta que estas retribuciones del alumnado no han sufrido ningún cambio sustancial desde mil novecientos noventa y dos que se aprobó la ley de policía es decir son las mismas

anteriores lógicamente actualizadas con las actualizaciones que corresponden al sueldo del personal como se ha dicho la promoción veintiocho son setecientos cuarenta y tres euros brutos al mes con la paga extra prorrateada pero vamos a mirar otros cuerpos policiales

un desfase económico vamos a ver cuál es la situación de los cuerpos mencionados en intervención en la guardia civil

se les abona setecientos euros al mes si bien de esta cantidad se les descuentan los servicios de desayuno comida cena y lavandería eta katalunian mossoek

euro por lo tanto no hay tanto desfase

y que el periodo de formación es una fase más de la serie de pruebas hasta ser funcionario de carrera

de trescientos cincuenta personas suspendieron el curso de formación treinta personas para la forma de determinación de la cuantía de la retribución del alumnado durante su periodo de formación nos tenemos que ir a la ley vasca de policía esa señora llanos que aprobamos su quinta modificación hace apenas cuatro meses en esta cámara concretamente el veintisiete de junio y más concretamente al apartado

que como funcionarios en prácticas percibirán una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo de clasificación de la categoría en que aspiren a ingresar es decir que el alumnado de la veintiocho promoción durante su periodo de formación en arkaute los nueve meses les corresponden según este artículo de la ley vasca de policía

para la promoción veintiocho es el ce dos beraz artikulu honek horrek

eusko legebiltzarrak este artículo señora llanos deja claro quién establece su retribución no es ni el departamento de seguridad ni la señora beltrán de heredia quien lo establece sino que es precisamente

en el texto de la ley de policía vasca y en este caso curiosamente su reciente modificación ha sido con el apoyo del grupo parlamentario proponente de esta iniciativa del grupo popular y luego es la ley general de presupuestos también aprobada por este parlamento la que establece las cuantías concretas anuales de las retribuciones que corresponden a cada grupo

por el grupo popular y su urgencia se podría pensar que esta es una cuestión que por lógica tuvo que estar sobre la mesa dos meses antes en el debate de la aprobación de la ley vasca donde se fijan precisamente estas retribuciones pero revisando las cincuenta y siete enmiendas presentadas por el grupo popular en concreto

al artículo cincuenta y cuatro de dicha ley ni de lejos que como decíamos en su apartado segundo es el que fija cómo se determinan esas retribuciones de los alumnos que ahora

que el salario mínimo interprofesional por qué no lo planteó como enmienda en su momento y no se crean también el grupo parlamentario elkarrekin podemos que

dice que no son condiciones laborales dignas pues tampoco señora garcía presentó ninguna enmienda a dicho artículo cincuenta y cuatro del proyecto de ley no bajaron a la tierra de su concepto de seguridad

puntualizar que aquí se ha producido un avance al menos desde nuestro punto de vista y creo que también desde el suyo antes al comienzo del curso se entregaba todo el material impreso un material muy voluminoso

digital arkampus más sostenible medioambientalmente creemos que es

contribuyen a la sostenibilidad medioambiental pues esto son hechos como casi todos los logros se consiguen poco a poco grano respecto a lo que decía la señora llanos de que va disminuyendo los candidatos

intervención me reservaré para hacer referencia a ello y por eso señora presidenta termino finalmente el tercer aspecto que mencionábamos que planteaba la señora llanos con su iniciativa era que ambas cuestiones la petición de regular las indemnizaciones e incrementar las retribuciones

como usted bien sabe la mesa ciento tres el artículo ciento tres establece la representación sindical la participación de representación sindical en el acuerdo regulador y como bien sabe el decreto cuatro barra dos mil doce de diecisiete de enero aprobó

y como le ocurría con el decreto de indemnizaciones tampoco aquí tampoco aquí se corresponde con lo que pide porque este decreto nada más empezar en su artículo primero relativo al ámbito personal establece que el acuerdo es aplicable al personal funcionario en prácticas en un proceso de ingreso al cuerpo de la ertzaintza una vez que hubiera superado el curso de formación

desempeñando puesto de trabajo están expresamente excluidos del convenio de la ertzaintza por lo tanto

esta es una materia que no entra dentro del ámbito de negociación de la mesa ciento tres por lo tanto por coherencia responsabilidad y seriedad

y a favor de la presentada conjuntamente con el grupo socialista que también creemos que es más concreta y atinada que la presentada por elkarrekin podemos a la que también votaremos en contra

queriendo dar respuesta a un problema muy concreto muy parcial arranca de una cuestión previa y general que es

de previsión del departamento para predecir y prevenir una situación

vinculado además a otra cuestión que es el objetivo no suficientemente explicado

las circunstancias de la evolución de criminalidad sean cuales sean la tasa de delincuencia sean cuales sean las necesidades de seguridad y sea cual sea la realidad presupuestaria la plantilla de la ertzaintza tiene que ser siempre y en todo lugar de

un máximo no es el techo sino es el mínimo tiene que ser ocho mil y punto

para establecer una moratoria con respecto a la veintisiete promoción porque nadie nos acababa de explicar la necesidad desde argumentos sólidos de hacer aquella convocatoria y algo que se prorroga o que se

agrava tal vez con la veintiocho convocatoria porque como décimos

en cinco años lo cual tenían que generar sí o sí un problema de gestión es un problema que se formulaba ya en la universidad en la facultad en el primer día de la asignatura de economía

como recursos limitados para afrontar necesidades infinitas y es

lo que nos encontramos recursos finitos recursos limitados recursos económicos limitados recursos de infraestructuras también limitados

y ahora en cierta manera nos llevamos las manos a la cabeza y no dan cobertura a esas necesidades que se habían estimado desde nuestro punto de vista de forma errónea gobernar efectivamente es tomar decisiones y se adoptó una que era saturar arkaute

para mantener el ratio policial y ahora nos lamentamos porque de la gestión de esa decisión nos estamos encontrando con problemas

y que el costo económico que esto supone para darle una solución

y un segundo argumento que quiero poner encima de la mesa porque es un problema de oportunidad porque efectivamente ahora nos damos cuenta del problema pero señora llanos usted no lo hizo cuando

cuando tenía usted la sartén por el mango porque se lo he

el proceso legislativo y usted en aquel momento no lo reclamó y ahora parece que nos encontramos con un problema que a usted le afecta muchísimo

en aquel momento convirtió el debate del modelo policial en una mera estipulación corporativa de los complementos de carrera profesional

convenio laboral y tal vez ese es el problema que usted en cierta manera vio que ahí podía conseguir

intenta ya posteriormente al debate de la ley ver si también puede arrancar algún tipo de compromiso al gobierno en este sentido pero ha pasado el momento y ha pasado el momento y yo creo que se lo ha explicado muy bien además el señor zorrilla porque usted no presentó

es la que obliga a que las cosas ahora se estén haciendo como se tienen que hacer

con el periodo de práctica

y yo creo que son dos momentos que en esta ley aparece además absolutamente claro porque a cada uno además le da una entidad retributiva remuneratoria completamente distinta

tienes acceso a retribuciones complementarias y

la ley aquella fue su oportunidad y me temo que

un cambio legislativo o tal vez igual se podrá poner algún parche pero

voz de los sindicatos y algunos además tengo que reflexionar que han propuesto algunas soluciones que habría que catalogarlas de verdaderas ocurrencias como aquella que

solicitando al ministerio de defensa para que los aspirantes a la ertzaintza se hospedaran en el acuartelamiento militar de araca

pero tal vez visto con perspectiva hubiese sido mejor tenerles acantonados para evitar un

cuando fueron detenidos haciendo puntería con una pistola de gas

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos

por la representante de elkarrekin podemos que señalaba ponía de manifiesto

que mi defensa demostraba un amor a la policía

siento por lo que siento y por quien lo siento reconocimiento y agradecimiento a la ertzaintza por la defensa de los derechos y libertades de todos los vascos

que estamos en campaña hombre es que como sigamos así no vamos a poder nunca decir nada porque estamos en campaña continua y permanente

en junio cuando se debatió la ley yo dije lo mismo y hasta

se podía ver que a lo mejor había porque no se formaba gobierno pero no había campaña

le tiró la pedrada o quien tiró al agente de la policía nacional

en el hospital se hizo daño en un dedo pero yo desde luego no me voy a solidarizar con él

que no me voy a solidarizar y habla yo a usted le he ofrecido llegar a un acuerdo

porque de verdad es que su iniciativa que es insta a brindar condiciones laborales y retributivas dignas

mire es que ya siento repetirme pero es que es una enmienda absolutamente que plasma lo de y la paz en el mundo

no no baje a la situación de los alumnos de la veintiocho y arbitre medidas para la veintiocho y yo le he ofrecido

llegábamos a medidas concretas para la veintiocho poniendo esta declaración de intenciones de pájaros y flores al principio porque no es más que eso y luego concretar eso

pero luego concretarlo y no ha querido entrar no ha querido entrar señora garcía el papel y

pero luego ahí está no ha querido entrar no sé si porque no quiere pactar una cuestión relativa a la policía con el partido popular o por el objeto yo no sé si fueran otros funcionarios en práctica y la situación de otros funcionarios en prácticas porque sí son funcionarios en prácticas

si usted hubiera hecho lo mismo si quinientos ochenta y cinco euros le parece suficiente

porque tengo una nómina ahí son quinientos ochenta y cinco si eso le parece suficiente pero bueno usted

o los funcionarios en prácticas luego no van a ser trabajadores decían que si se necesita que

con necesidades del personal mire esto es lo que hay en las comisarías en las comisarías tienen estos dos carteles

si usted la espera para ser atendido puede ser prolongada y si no desea esperar usted puede solicitar una cita previa en cualquiera de las dependencias de la ertzaintza en bilbao esto es de bilbao o sea es decir vuelva usted mañana realizar la denuncia por internet

o lo que decía yo antes hágase su denuncia interponer la denuncia en estas dependencias

estas son las condiciones en las que tienen que trabajar porque le decía yo antes

el ciudadano ha estado dos horas y pico esperando pues la verdad es que en muy buena sintonía no llega

beltrán de heredia no se la lleva el agente que está recogiendo la denuncia luego yo no sé

tanto ciudadanos como ellos tengan unas condiciones

desde luego que sí bien señores del partido nacionalista vasco evidentemente yo no sé si es que aprobamos la ley

en junio y esa ley ya no sé igual es que como se prevé que tiene que durar otros veinte años más

claro que nosotros hicimos nuestra enmienda por cierto que esta situación no surge en junio en junio la aprobamos cuando se hicieron las enmiendas no pero además en cualquier caso cosas que

cambiar independientemente de que se haya aprobado la ley se podrán plantear ustedes se permiten

al señor prieto por el tono probablemente yo comprendo perfectamente que al final uno de los grupos que apoyan al gobierno

hubiera podido llegar a un acuerdo con ustedes no creo señor zorrilla por qué

dar lecciones a los demás y hablan siempre de las condiciones en el estado español y del hecho diferencial vasco y de que si tuviesemos la competencia nosotros cómo sería apoyaron los novecientos euros del salario mínimo interprofesional y

para esto la tienen y usted me ha hecho la comparativa con otras policías que por cierto todas cobran más porque

todos los que ha dicho cobran más todos cobran más vale

por qué no me lo compara con las policías locales porque las policías locales

en este momento en arkaute un aspirante a policía local igual aspirante a policía local aspirante a ertzaina uno cobra todo el otro quinientos ochenta y cinco ya le digo ni la

se han gastado no hay dinero para pagarles a los de la veintiocho pero se han gastado ciento catorce mil euros en modificar cincuenta coches

no caben y esto también es una mala gestión del departamento porque no creo que los agentes hayan crecido de repente ni los coches encogidos de repente luego

agentes que están estudiando para hacer atractivo porque si no
al final todos van a ir a la policía local y vamos a tener problemas para cubrir las plazas de la ertzaintza eskerrik asko eskerrik asko llanos anderea

andrea primero voy a hacer referencia a algunas cosas que ha manifestado el señor

cuando habla de falta de planificación del departamento de seguridad para

su planteamiento de moratoria de la veintisiete queda claro que no ha habido falta de planificación ni mucho menos que la situación es inasumible pues no creo que tampoco sea una situación dramática la que se vive actualmente en la academia más bien al contrario

y la policía vasca y también se lo digo a la señora llanos está compuesta

y creo que actualmente contamos con una policía vasca la mejor preparada de la historia dice también que

digamos donde destina la mayor parte de enmiendas parciales del mismo y finalmente una afirmación que me parece muy interesante y compartida dice que los recursos

yo lo comparto y creo que esto también es aplicable a otras muchas

al partido popular antes me he quedado porque no tenía tiempo respecto a algunas cuestiones que planteaba en su primera intervención que iba a hacer ahora mención decía que el número

atractivo a ver se pueden hacer afirmaciones pero hay que contrastarlas con datos no ha facilitado ningún dato al respecto le voy a dar datos yo le voy a dar datos en la promoción veintisiete

solicitudes y luego se presentaron al examen dos mil seiscientos treinta y cinco personas un setenta coma cuarenta y tres por ciento la veintiocho se presentaron cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho es decir un veinte por ciento más que la promoción anterior

como las personas que luego finalmente se presentan y este dato el de la veintiocho el setenta y cuatro coma setenta y dos por ciento es el más alto de la historia

y también de las convocatorias unificadas de policía local que para su información la última la del diecinueve

presentado el sesenta y cinco coma cuarenta y seis por ciento por tanto ese dato no es cierto no van disminuyendo sino que van aumentando con datos señora llanos respecto a lo que decía si es atractivo ser agente de la ertzaintza que no se cubre el número bueno ya se lo dijo la señora consejera en la pregunta oral aquí en esta misma cámara se presentan los que he mencionado y luego se eligen a los mejores si no hay esas personas capacitadas para ser

pues en las siguientes promociones esperemos que las haya pero no se trata de rellenar por rellenar ese número hablaba también de la plantilla bueno la plantilla pues como se suele decir excusation non petita

hablaba del agravio comparativo con las policías locales dice que reciben el sueldo de los agentes que ya están en la calle le vuelvo a decir afirmación absoluta todos y todas las agentes de policía local

la mayoría cumple la ley la mayoría de los ayuntamientos cumple la ley sí que es cierto que fruto de la autonomía local

ayuntamientos que han llegado a distintos acuerdos unos pagan los trienios

la justicia posteriormente les ha dicho que no es correcto

desde aquí eudel también está haciendo una petición de que se regularice la situación pero eso no creo

la segunda intervención la verdad es que ha sido desconcertante y

también es que no tenía ningún argumento para rebatirlos todo lo basaba en un decreto que no se aplica al alumnado de la

usted aprobó y que no enmendó no enmendó no mienta podrá decir lo que quiera pero no mienta aquí están todas las enmiendas que se presentaron

ha dicho que enmendó ah bueno pues entonces eso es por eso le iba a decir dígame

del mismo decía de las fechas pues bueno yo creo que en este tema usted hizo una pregunta

y la ley se aprobó el veintisiete de junio lógicamente no

el acta del pleno donde se debatió la ley y a pesar de que este es un tema que ya había tratado quince días antes no hizo ninguna referencia a él en ese pleno por tanto

yo la verdad es que de eso no estamos hablando hoy y la verdad lo que plantea creo que

pida que le pasen toda la información para que pueda mantener unos argumentos mínimamente sostenibles y solventes eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

bai ez naiz gehiegi luzatuko había una cuestión que me quedaba pendiente

porque se ha querido referir a ciertos otros colectivos de funcionarios pero

el sistema de becas que ha sido recientemente cercenado por decisión del tribunal supremo y ahora son las de bachillerato y fp pero anteriormente fueron las becas a las ayudas universitarias y ahí se entiende que la formación universitaria corre a cuenta de las familias pero el periodo de formación en la ertzaintza no solamente tendría que ser subvencionado que no me parecería del todo mal sino que además retribuido

condiciones que los funcionarios que están prestando servicio y si no indemnizados

de agravio en este tema

planificación que se han tomado medidas etcétera hombre falta de

porque yo entiendo que se puede saber cuándo van a venir las jubilaciones es decir miras la edad de los miembros de la ertzaintza y te sale cuáles se van a jubilar

y en base a eso organizas entonces la reposición

de forma organizada de forma escalonada de forma progresiva pero es la imagen que a mí no me da cuando en cinco años se llaman

además siempre sobre el mismo colchón de aspirantes quiero decir los que no han pasado la primera se vuelven a presentar

y la calidad también de quienes se están presentando imagino que se va resintiendo es buena previsión

efectivamente recursos que no son infinitos para necesidades que se nos puedan ocurrir infinitas y en cierta manera pues claro de algún sitio habrá que recortar si quieren mantener ocho mil funcionarios a pleno rendimiento dentro de la ertzaintza

si como parece que me quiere reprochar la señora llanos

y yo le preguntaría a la señora llanos entonces podríamos quitar dentro del departamento por ejemplo la brigada móvil les podríamos restas efectivos le podríamos restar en materiales podríamos restar armamento

porque ustedes siguen haciendo loas a las actitudes de brutalidad policial ustedes siguen aplaudiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que han realizado actuaciones
de vulneraciones de derechos humanos y ustedes siguen haciendo apología de actuaciones de violencia inaceptable por parte de estos cuerpos policiales eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

aurrera egiteko señorías en los últimos años en los últimos treinta años la cooperación vasca descentralizada al desarrollo ha sido para muchos pueblos instituciones y movimientos sociales de euskal herria y del mundo un signo de compromiso y solidaridad internacionalista teniendo como base los principios de derechos humanos y las alianzas público sociales como base

que la ha diferenciado de otras teniendo siempre como base como decía los derechos humanos la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres pero como todo

son fundamentales bajo una cuestión y son los recursos los recursos

no se puede asumir el borrador que nos han presentado no se puede asumir porque supone un brutal recorte presupuestario en materia de cooperación y no es que lo digamos nosotras señorías lo dicen las más de ochenta ong que componen la coordinadora de ong de euskadi

cero coma cuarenta y uno por ciento del cero coma siete por ciento establecido por la ley vasca de cooperación una ley que en su momento supuso un gran consenso social

ninguneada la política de cooperación es una política social y por tanto los recortes que se van a dar no tienen otro nombre que el de recortes sociales señorías recortes sociales que son injustificables desde la perspectiva de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos la cooperación vasca constituye una política en sí misma no se trata de un conjunto de medidas o actividades puntuales ligada a asistencialismo a la caridad o a las épocas de bonanza como se pretende hacer ver

ha manifestado que estos recortes tendrán una clara traducción humana una clara repercusión en materia de educación

acceso al agua potable sistemas de saneamiento lucha contra el hambre y sus causas en miles de personas que viven

recortes que suponen un claro frenazo a la capacidad transformadora de esta política que busca

atajando sus causas y paliando sus consecuencias en las poblaciones más vulnerables también se van a ver afectadas iniciativas de nuestro entorno que buscan precisamente una sensibilización y una masa crítica en la ciudadanía vasca asimismo tal y como han indicado las trabajadores y trabajadores del sector muchas

peores laborales sabemos además que en su mayoría son mujeres y jóvenes por tanto sumamos precariedad a precariedad

en los que estamos hablando de una crisis ecológica una emergencia climática y sostenimiento del planeta una desigualdad estructural entre hombres y mujeres miles y miles de personas desplazándose forzadamente guerras hambre y precariedad

en los que tendríamos que verdaderamente estar a la altura de las circunstancias y mostrar esos valores que siempre han caracterizado a la cooperación vasca politikak lantzerako orduan

paralización y retroceso de muchos proyectos de cooperación en muy diferentes países como hemos dicho en esta gran trayectoria de la cooperación también la desaparición

de la cooperación en el marco de la ciudadanía crítica corriendo el peligro de mensajes populistas como primero los de aquí

compromiso ético y político que siempre ha caracterizado a la cooperación arazo larria urtetan eta urtetan beste kontinenteetan latinoamerikan adibidez irekitako prozesu

más vulnerables es irrenunciable acabar con la pobreza y la exclusión es una obligación señorías una obligación de las personas que conformamos esta cámara no se está cumpliendo en primer lugar con la presentación de unos presupuestos que no son ni sociales ni solidarios en materia de cooperación y que por tanto merecen desde luego un cambio

esto como todo es cuestión de voluntad política de voluntad política que queremos que se vea hoy reflejada en esta cámara

una propuesta que ha sido modificada y ha sido modificada

en la misma y tenga una herramienta de acción política

por su apoyo a la iniciativa y también al señor barrio por votar favorablemente a la misma instamos

de idea a que dé un paso adelante y a que muestre la voluntad de llegar a un acuerdo que supone sin duda un gran paso y un gran avance en la política pública vasca de cooperación descentralizada aprovecho brevemente para hacer una serie de apuntes que me parecen muy importantes

de la coherencia de políticas para el desarrollo del gobierno vasco

que no es posible por ejemplo que estemos favoreciendo empresas que comercializan y venden armas para acabar con la población civil en yemen y que paralelamente

estos no son coherencia de políticas para el desarrollo y por tanto merecen repensarlas y merecen otro

como tampoco lo es la estrategia de internacionalización de las empresas del gobierno vasco una estrategia que como bien saben y los estudios de instituciones académicas de mucho prestigio han llevado a cabo

humanos señorías los derechos humanos en la internacionalización de las empresas en las que las empresas vascas se están asentando

no solo señorías en el ámbito de los recursos económicos tan importantes para esto que estamos poniendo hoy de manifiesto sino que además es importante como por ejemplo el consejo vasco de cooperación un órgano que tendría que tener una evolución constante tendría que tener una capacidad decisoria elevada y que sin embargo año tras año

que son meras visualizadoras de lo que está pasando se les informa tarde no se atiende a sus peticiones incluso

de dicho órgano exigido tampoco señorías vale el argumento de unos presupuestos prorrogados unos presupuestos prorrogados que mientras han sido prorrogados aludiendo y apelando a la solidaridad

bajando un veinticinco por ciento a ese recorte sumando recorte a recorte un veinticinco por ciento de recorte

de proyectos con la repercusión que eso conlleva piénsenlo ustedes

tener un desarrollo y en este sentido mientras pasa esto resulta que la agencia vasca de cooperación al desarrollo incrementa sus gastos de funcionamiento en un cuarenta y cuatro por ciento

qué modelo de cooperación queremos es que esto es muy raro porque cuando se reducen los proyectos de cooperación y asimismo se incrementa el gasto en la agencia de cooperación

quiere decir que se quiere sustituir señorías y esto es muy grave a las propias organizaciones sociales y a su trayectoria para ejercer el trabajo de otra manera y esto díganlo sin tapujos lo tienen que decir porque hay cientos y cientos de personas que quieren saber qué va a pasar con su situación y no solo eso sino que recordemos que por ejemplo en dos mil diecisiete se llegaron aproximadamente

en todo el mundo con los procesos de transformación social llevados a cabo por la cooperación vasca por tanto queremos una explicación queremos saber y queremos que lo digan sin tapujos ustedes realmente cuando están apelando a la sociedad civil a que se mantenga y a que se contenga

dichos gastos ese es el problema la orientación y en la orientación es donde tenemos un grave problema la orientación de la política pública que hasta ahora ha garantizado que la cooperación vasca se defina por una estrategia público social parece que ahora la queremos además con una estrategia público privada con un incremento muy

ni siquiera pueden concurrir en igualdad de condiciones a los concursos

creo que está muy claro que si hay voluntad política se puede hacer pero además de los recursos vamos a hablar claro qué tipo de política de cooperación queremos llevar a cabo

qué es y cuál es la realidad de la política de cooperación actualmente eskerrik asko urrea

eskerrik asko ríanse señoras y señores del pnv todo lo que quieran los cambios profundos tardan en llegar pero llegaran también aquí en chile han tardado treinta años en despertar y salir a la calle y también aquí

hastea horrekin con esa solidaridad que es la ternura de los pueblos

críticos porque si no es un mero lavado de cara porque

con quién somos solidarios norekin gara solidarioak

solidarios somos solidarias con las victimas del sistema de este sistema económico un sistema económico que es

y del planeta solo voy a dar un dato la mitad de la riqueza del planeta está en manos del uno por ciento de la población ese es el dato que ilustra lo que es el sistema en el que vivimos

que en euskadi consume más de siete veces de recursos de los que

funcionar y que crea víctimas de vidas precarias en el norte y que ahoga las vidas en el sur esa es la lógica perversa del sistema y

en ser solidarios con esas víctimas de las que hablaba ser solidarios con las víctimas de la lucha de los pueblos del mundo en defensa de sus recursos naturales

europea de multinacionales y la gente que está en la comisión de derechos humanos o en la comisión de acción exterior seguramente estará hasta cansada de recibir

que vienen con problemas de desplazamiento que vienen con problemas de

comunidades y curiosamente siempre dicen algo en común el desarrollo

eso es lo que al fin y al cabo está en el germen de todos los problemas

en el mismo nivel al opresor y al oprimido como hace por ejemplo una enmienda del partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi a una propuesta no de ley

palestino jamás podremos poner en el mismo nivel al opresor y al oprimido

porque nadie está exento de tener contradicciones no nos vale seguir con aquello de hombre blanco

ayudar que es el modelo que algunos tienen en la cabeza no podemos seguir con una política de cooperación avanzada

podemos mejorar podemos mejorar mucho en esa cooperación pero no podemos seguir con esa cooperación avanzada eta aldi berean gure gizartean konpetentzia

y es importante hablar de coherencia de políticas porque están

en dos compartimentos bastante estancos porque la agencia vasca de cooperación apoya

empoderamiento de pueblos indígenas y campesinos por ejemplo en colombia en el cauca voy a poner un ejemplo que es ese pero a la vez se calla cuando un proyecto

de personas y con el modo de vida de miles de personas

igual alguien me pregunta por qué el gobierno vasco tiene que decir algo sobre un proyecto hidroeléctrico que se hace en colombia

hay un banco que se llama banco bilbao vizcaya argentaria que tiene sede fiscal en bilbao

hace como no tenemos el plan de empresas y derechos humanos tampoco sabemos cuáles son las intenciones del gobierno en ese sentido

cuando viene aquí la señora tapia y dice que como hay otras empresas que violan el derecho internacional en

por qué no empresas vascas van a hacer lo mismo por qué nos vamos a quedar

de qué sirve apoyar proyectos que sustentan la ocupación de israel y luego

creo que si vamos a gastarnos dinero en paliar la situación de los refugiados palestinos no contribuíamos por acción o por omisión a su situación o por eso se revuelven y a eso estamos muy acostumbrados en la comisión también cuando vienen pueblos por ejemplo como

brasil y menciona otra empresa con sede fiscal en bilbao o como vienen los pueblos de méxico y la semana que viene vendrán con el proyecto

que está detrás de esos proyectos y aquí todo el mundo se revuelve pues algo de coherencia tendremos que tener o con una propuesta que hicimos bastante moderadita que era

a realizar un esfuerzo de transformación a corto

bélica que hay en euskadi si no lo cambiamos seguiremos teniendo estos problemas de coherencia

rechazadas tanto de elkarrekin podemos como de otros grupos y en este caso

de eh bildu pero ya que la señora urrea ha explicado

en junio en esta tribuna se dijo que iba a venir un plan de empresas y derechos humanos no sabemos nada de él yo hasta vi la portada pero no sabemos nada de él no sabemos qué pasa no sabemos si tienen

más información sobre ese plan que tanto se vendió hace escasos meses no sé si la señora tapia lo estará parando si hay tapias más grandes aún entre lehendakaritza y el departamento de desarrollo económico

que una política que tiene el consenso mayoritario del pueblo vasco se vea recortada año a año y se vea incumplida una ley

otra ley y que está estableciendo un porcentaje además que no se viene cumpliendo y no sé

algún tipo de innovación en la justificación para que no se cumpla el cero coma siete por ciento

en esta legislatura pero bueno les invito a ver los datos de recaudación de las haciendas forales y de lehendakaritza pero ni siquiera me parece que tengamos que comprar del todo ese argumento porque

eso es lo que dice la ley pero más allá de la ley que viene muy clara en la transacción lo que queremos a través de esa ley insistimos en que es importante ser coherentes yo el primero y espero que así por eso

de políticas para que entre todos seamos capaces de consolidar una política más allá del tema presupuestario que insisto es la base también para los futuros acuerdos y si no se cumple nosotros no vamos a estar en ningún otro acuerdo eskerrik asko

días buenas tardes ya a mí me gustaría pronunciarme en lugar

desde el que lo ha hecho el señor martínez desde el lado positivo desde el lado positivo que todos conocemos en relación con la cooperación

profundizar desde luego desde ese lado positivo en la cooperación vasca esta es una cuestión relevante nosotros desde el grupo popular siempre le hemos dado mucha importancia en

de esta cuestión y hemos reconocido siempre y lo hemos dicho la solidaridad vasca ha sido ejemplar es ejemplar organizaciones cívicas organizaciones sociales la iglesia las organizaciones a su alrededor u organizaciones no gubernamentales los misioneros

médicos sanitarios es decir ha sido un factor

y que nosotros desde luego queremos defender y queremos propiciar y mantener desde luego también hemos podido escuchar en este parlamento y recientemente las opiniones y las propuestas de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a través de su coordinadora en diferentes momentos el más reciente el dieciséis de septiembre de este mismo año no en este parlamento también nos hemos pronunciado

veintiuno de cooperación para el desarrollo en la comisión de derechos humanos hace dos años y ahí

una serie de propuestas de resolución hemos conocido el plan director de cooperación al desarrollo dos mil dieciocho dos mil veintiuno hemos escuchado explicaciones también de la agencia vasca

en esa fecha en el que comparecieron las organizaciones no gubernamentales no estamos hablando de nada distinto en este momento

las propuestas de resolución esas treinta y cinco propuestas de resolución de la comisión de derechos humanos

esas orientaciones generales unas orientaciones interesantes muy interesantes que dieron lugar al plan director mencionado y en el que nosotros grupo incluía

y aún entendemos nosotros y así lo hemos hecho cada vez que hemos podido que se pueden seguir haciendo mayores esfuerzos económicos en relación con esta cuestión y nosotros no vamos a hacer otra cosa lo vamos a aprovechar también a hacerlo en este momento

lo aprovechamos cada vez que podemos el poder aumentar el poder incidir en la mayor cantidad económica en relación con la cooperación al desarrollo no vamos a hacer otra cosa que lo que hemos hecho

del dieciocho y la prórroga con aumentos desde luego en el presupuesto en relación

inicial en el plan director donde también nosotros incluíamos para los cuatro años aumentos en relación con las partidas tratar de aumentar esos fondos es lo que hoy también podemos entender

pues también tenemos que seguir profundizando vuelvo a decir abordando la cuestión desde un carácter positivo y de desarrollo y de posibilidades

y no negar que esa posibilidad está ahí desde luego

podamos entender como responsable como factible ampliar los fondos de cooperación en propuestas

que pueda trabajar esta comunidad esta comunidad autónoma a través de sus recursos y lo fundamentamos también en lo que es la propia ley vasca de dos mil siete

y desde luego desde nuestro punto de vista ese es el camino que marca y por donde nosotros queremos discurrir también incluso en las propuestas que a veces pueden incomodar un poco al gobierno o pueden hacer que el gobierno pues no las entienda muy bien no las encaje muy bien en una dinámica presupuestaria pero que nosotros entendemos que son factibles que le moleste un poco al gobierno

lo hemos hecho creo que para el gobierno además para los grupos que apoyan al gobierno el texto propuesto no está mal

está bien las propias propuestas de resolución que le quiero recordar a ustedes

se enmarcan en el mismo sentido que estas propuestas de las que podemos estar hoy hablando en este momento se enmarcan en el mismo sentido

una clarísima relación con la propuesta catorce el parlamento vasco insta al gobierno vasco a no abandonar el esfuerzo de incremento de fondos para la cooperación al desarrollo ni renunciar a avanzar en el compromiso de alcanzar el cero coma siete del presupuesto disponible

por necesidades si yo lo puedo entender si además lo puedo compartir

son compromisos que ustedes ya han asumido en ese sentido

que se puede alcanzar bueno ya nos lo explicarán enseguida no yo también agradezco a los firmantes

de transacción la reformulación yo creo que los puntos de la propuesta original hay materias para otros debates

independientes del tema de la económica o de la presupuestaria yo creo que hay otras cuestiones que tienen relevancia en relación con los criterios en relación la responsabilidad de las empresas en relación con otras cuestiones que si se mezclan mucho a veces

y la podemos plantear en este momento es decir la propuesta de transacción al final lo que trata de hacer y que vamos a apoyar es reconocer la trayectoria de la cooperación vasca y lo he dicho yo al principio de mi intervención al gobierno vasco a asumir la política de cooperación al desarrollo como una política pública consolidada yo también creo que lo hace pero instar a esas cuestiones

seguir instando en el marco de lo que estamos hablando a que realice esa política pública consolidada estable que se fortalezca y se ejecute compartida con las asociaciones

nos han pedido las organizaciones no gubernamentales que nos pronunciemos en ese sentido de una manera más

la tercera está claro que es nuestra enmienda que el parlamento vasco inste al gobierno vasco

aumente las partidas de cooperación al desarrollo pues nosotros lo hemos hecho cuando hemos podido la negociación y lo seguimos haciendo

enmiendas y ese fondo de cooperación se verá incrementado con las enmiendas

las vamos a presentar así que independientemente de que no haya acuerdo de presupuestos se pueden aprobar las enmiendas que presentemos al aumento de fondos de cooperación del desarrollo la última es recordar que tenemos dos leyes

cómo se enfadan ustedes cuando se habla de presupuestos y de las negociaciones

es mi turno de palabra el parlamento vasco

las dos leyes del dos mil siete están ahí y bien instar a que se cumplan pues es lo normal

yo creo que en el marco de este acuerdo vuelvo a decir había otras cuestiones hemos tratado

en otro momento en otros debates pero aquí nos hemos centrado en el esfuerzo económico
y nosotros les pedimos que hagan un esfuerzo nada más muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal

gracias presidenta buenos días lehendakari

hoy se nos trae a debate en este pleno una iniciativa de eh bildu sobre la importante de la cooperación vasca enel desarrollo desde el grupo

decir y lo primero que tenemos que decir es que la formulación de la proposición el título de la proposición nos parece impecable partiendo como partimos de un reconocimiento expreso

siempre a la cooperación básica nos parece impecable yo creo que es pacífica la consideración de que las políticas de cooperación en nuestro país son políticas públicas consolidadas y estables que han alcanzado además un altísimo consenso no solamente entre partidos políticos sino también entre la propia sociedad vasca

de esto no es otro que estas políticas buscan promover y colaborar a construir un mundo mejor un mundo donde las condiciones básicas de igualdad paz justicia y libertad alcancen a todas las personas

más vulnerables son políticas también que inciden en la vigencia y promoción como no puede ser de otra manera de los derechos humanos en cuanto que estos

angular sobre la que se sustenta la estructura ideológica

una cooperación que para nosotros no puede entenderse sino para un desarrollo eficaz sostenible

adecuada a los recursos disponibles centrada en los ejes estratégicos de intervención y también porque son un signo de compromiso y solidaridad

la solidaridad internacionalista y la constatación de la necesidad de adaptación

años pretenden caracterizar un nuevo modelo que sea nuestro también teniendo en cuenta la responsabilidad común en la defensa de los derechos humanos

y la sensibilización de la ciudadanía vasca para lograr un mundo más justo así que coincidimos yo creo que todos en lo que es la iniciativa ahora hay que decir efectivamente que como también ha recordado el señor barrio

de julio de dos mil dieciocho el consejo de gobierno acuerda el cuarto plan director de cooperación para el desarrollo dos mil dieciocho dos mil veintiuno

se cuenta con las orientaciones generales a las que también ha hecho referencia el señor barrio de la planificación estratégica plurianual dos mil dieciocho dos mil veintiuno

plan director dos mil catorce dos mil diecisiete así como efectivamente las treinta y cinco resoluciones que se aprobaron en la comisión de derechos humanos de este parlamento tras el debate de dichas resoluciones y de dichas orientaciones generales que se sustanció también el veinte de diciembre de dos mil diecisiete ha pasado poco más de un año desde la aprobación

a nuestro juicio aunque todo es mejorable y perceptible se va caminando con un paso sostenido para afrontar los retos que se nos plantean ahora y a futuro

por un lado consolidar la política de cooperación dotándola de recursos suficientes

apostar en el avance en la coherencia de las políticas para el desarrollo fomentar la coordinación tanto intra como interinstitucional ampliar la base social y la corresponsabilidad promoviendo las necesarias alianzas y sinergias así como

impulso mantenido de una promoción de una ciudadanía crítica

en definitiva se trata de avanzar en el desarrollo del propio plan director que establece todo esto de lo que vengo hablando así como avanzar en la estrategia vasca de cooperación para la transformación social

dos mil treinta que como saben también busca el impulso de la sensibilización de la ciudadanía el enfoque

el señor martínez y todo ello impulsando aportaciones conjuntas de nuestras instituciones

y otras organizaciones y movimientos a los procesos educativos que contribuyan realmente a una transformación social en la que el respeto a los derechos humanos unas relaciones equitativas de poder sean una realidad en este mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir

pero en estos últimos años la cooperación vasca no ha dejado de ser un referente importante y este plan y todas las actuaciones que se están haciendo van ese camino y por eso insisto

es correcta nos parece perfecta pero que hay que reconocer lo que se está haciendo

nuestra enmienda de totalidad que consideramos que es más realista más justa más a pie de la realidad

analizando un poco yo plantearía fundamentalmente dos cuestiones primero en relación con las dos cuestiones que se reseñan en los puntos uno y dos

obviamente la primera yo creo que no cabe duda del reconocimiento a la cooperación en estos treinta años y también habría que decir que bueno bien efectivamente aquí se habla de impulsar que el gobierno vasco asuma

todas estas cuestiones señora urrea y respecto del punto tres

de totalidad que hemos presentado entendemos que debe proseguirse con el incremento anual destinado a cooperación

de que para el grupo socialista así como creo que para el resto de los grupos de esta cámara

es un aspecto irrenunciable quiero recordar que en la vida

y en este país el único momento en que se llegó a ese porcentaje fue en el gobierno socialista de patxi lópez en una situación económica bastante

en fin crítica yo creo que hay que avanzar y ese es el planteamiento que desde nuestro grupo se hace sin

pero bueno también ahí están las

proponer propuestas de una manera franca y sobre todo también predicar con el ejemplo porque es muy fácil llegar aquí

no peras al olmo pero sí un esfuerzo que en otras instituciones no se hace y entonces en definitiva de lo que se trata es de que está muy bien todo esto

desde los grupos de la oposición para fomentar una negociación presupuestaria proactiva que permita diciendo de dónde se saca a dónde se mete

de ir incrementando como así se acordó en esa resoluciones y como así se reconoce en el propio plan director el aumento de

las aportaciones presupuestarias y finalmente respecto al punto cuatro

y desde luego lo que sí se está cumpliendo son con los incrementos previstos en el marco presupuestario del cuarto plan director y habrá que reconocer también

ha sido por una situación a la que usted ha hecho referencia de crisis sistémica que en estos momentos no será y que por lo tanto entiendo que va a poder ir superando las cuantías que vayan

nuestra enmienda de totalidad nos parece más correcta más realista y más justa y por lo tanto no podemos apoyar la transaccional

insisto aunque coincidamos en lo nuclear

incluso durante los años más duros de la crisis económica se ha mantenido la apuesta por la cooperación al desarrollo una apuesta que nos ha convertido en referente referente nuestro entorno sí

pero como bien saben ustedes es seña de identidad de las instituciones vascas y en especial del gobierno vasco no caer en la autocomplacencia prueba de ello es que desde el año dos mil trece hasta hoy se ha aumentado la partida destinada a cooperación al desarrollo año

la semana pasada conocimos de manos del sailburu azpiazu el proyecto de presupuestos del gobierno vasco para el ejercicio dos mil veinte qué pasa con la cooperación al desarrollo en ese proyecto de presupuestos se lo digo la partida aumenta

han hablado de recortes tres millónes más para un total de cuarenta y nueve millónes de euros de presupuesto en el proyecto de presupuestos todo en la línea de lo que establece las previsiones del plan director y es que

y escuchara los discursos de determinados grupos de la oposición esa persona pensaría que la situación en euskadi es un desastre esa persona pensaría por ejemplo

o regiones de su entorno en cooperación al desarrollo pero saben que pasa que la realidad dice que euskadi invierte más esa persona pensaría por ejemplo que la ejecución del presupuesto no ha alcanzado

pero saben que ocurre que la realidad nos dice que la ejecución del presupuesto el pasado ejercicio fue del noventa y nueve por ciento si cogiera el texto de la proponente esa persona pensaría que el gobierno vasco ha hecho absoluta dejadez en materia de sensibilización y concienciación pero es que la realidad es que en el año dos mil diecisiete se aprobó la estrategia dos mil treinta para sensibilización concienciación y educación para la transformación social y es que señora urrea

yo tampoco estaba pero sabe qué ocurre sabe qué ocurre que la actividad de este parlamento no empieza y termina con nosotros mismos nosotros podemos estar o no estar podemos ir o venir pero el país no se para las instituciones no se paran y la actividad del gobierno

yo me alegro mucho de que a usted le preocupe la sensibilización y la concienciación a nosotros también nos preocupa pero me congratula decirle que al gobierno también le ocupó le ocupó y le preocupó y le ocupó tanto que en el plan director se establece una reserva del trece por ciento de los fondos

hablan de convertir el trabajo interinstitucional en la seña de identidad de la cooperación vasca el trabajo interinstitucional

mire prueba de ello un ejemplo es el

saneamiento del agua en centro américa llevado a cabo en nicaragua y costa rica desarrollado por ura

más el portal de la cooperación pública vasca desarrollado por las tres diputaciones los ayuntamientos de las tres capitales y

ese portal perdona se nos presentó en la comisión de derechos humanos durante el mes de septiembre de manos del director de la agencia vasca

si todo esto les parece poco hay más el gobierno trabaja en mejorar los medios de la agencia vasca de cooperación en mejorar los medios humanos y técnicos efectivamente se trabaja en mejorar la sede se trabaja en mejorar la sede para que el equipo de trabajadores y profesionales de la agencia vasca de cooperación puedan tener un lugar acorde

y evidentemente se trabaja en mejorar el equipo técnico de la agencia efectivamente porque un presupuesto del nivel del departamento de cooperación al desarrollo merece un equipo mayor que el que tiene y

y señores la cooperación al desarrollo había sido hasta ahora una materia pacífica había gozado de cierto consenso

de los partidos hoy eso ha cambiado cuál ha sido la razón la situación en euskadi con respecto a la cooperación al desarrollo es hoy peor

no por lo tanto qué ha cambiado si la situación no ha ido a peor y hoy se invierte más que hace unos años por qué hoy se utiliza la cooperación al desarrollo

con la cooperación al desarrollo imagino que algo tendrá que ver el hecho de que esta noche empiece una campaña electoral pero esa es una pregunta a la que no tengo que responder yo es una pregunta a la que tienen que responder determinados grupos pero mientras ustedes responden yo me voy a permitir una licencia esa licencia que me lleva a decirles que si realmente quieren que aumente los medios

económicos destinados a la cooperación y al desarrollo tienen una oportunidad aprovéchenla este es su momento mire estamos a las puertas de una negociación presupuestaria

si realmente quieren que aumenten las partidas mójense mójense hagan propuestas hagan esfuerzos saben que ocurre miren la semana pasada un miembro de este parlamento amagó con utilizar un refrán finalmente se echó para atrás que decía y vuelta la burra al trigo pues yo voy a utilizar un refrán muy parecido muy parecido que tiene que ver con el mismo cereal y que viene a decir otra cosa y que describe muy bien la postura de determinados grupo de esta cámara

y otra dar trigo eskerrik asko eskerrik asko díez jauna

porque durante nuestra intervención sobre todo en la mía y la de elkarrekin podemos con este tema que supuestamente es tan serio

riéndose todo el rato sin hacer caso a lo que planteábamos creo que le ha faltada contarnos el chiste

efectivamente usted no estaba aquí yo estaba aquí en la pasada legislatura he sido la encargada de llevar este tema y he planteado políticas de cooperación muy importantes que han sido aprobadas por esta cámara pero que

ninguneadas sistemáticamente como el cumplimiento de la ley porque ustedes para lo que quieren son adalides del cumplimiento de las leyes pero cuando les compete cuando supone mojarse enfangarse verdaderamente pasan de ellas por completo y eso es lo que hay que denunciar en esta cámara señorías no es algo que este grupo parlamentario haya planteado porque sí porque se le ha ocurrido o porque pasaba por aquí

esa persona esa persona que pase por aquí verá qué es lo que realmente pasa no esa persona no esas cientos

a las que usted hoy aquí les ha faltado el respeto porque estas personas están dejando la piel se están dejando la piel para conseguir precisamente

se están dejando la piel a pesar de los múltiples obstáculos usted hablaba aquí de un incremento de tres millónes un incremento de tres millónes en una reducción del año pasado para este dos mil diecinueve cinco coma tres millónes menos en dos mil diecinueve incrementan tres millónes haga el cálculo supongo que podrá hacer

que hay un recorte brutal y es que además estos cinco coma tres millónes que recortaron para este presente ejercicio ya estaba recortado adicionalmente estamos en momentos

anteriores a dos mil ocho señorías cómo se le llama a esto estamos hablando y la señora gallástegui hablaba de palabras bonitas de consideración conjuntamente digamos tener una relación en este sentido y acordar y tener en cuenta esa identidad de la cooperación vasca pero es que señorías están ustedes también en el gobierno y no están haciendo nada y no se ha hecho nada tampoco cuando

dos mil dieciséis se plantearon propuestas importantes en esta cámara que además

a la incapacidad y que desde el partido nacionalista vasco ya les dijeron no no no no nos metan a nosotros porque miren les hemos dicho dónde quieren las partidas y dijeron no pónganos en lasarte

que salieron espantadas con esta situación no es una cuestión que traigamos porque sí es que es sangrante la situación les voy a recordar la carta que

incluso presupuestaria que no se acercaba a ese cero coma siete por ciento intentando ser generosas aunque ya está bien pero intentaban ser generosas y hablaban de un cero coma cuarenta y cinco por ciento para el ejercicio dos mil veinte

ustedes lo que tienen que hacer y al menos por deferencia a esas ochenta ong vascas subir un cuatro por ciento

que estamos a tiempo de enmendar en materia de cooperación van a ser ustedes capaces de ser consecuentes con esas palabras grandilocuentes que realmente en el día a día y donde tienen que estar parece que no están porque parece que solo están en esta cámara y que no han hablado

ha estado en la comisión de derechos humanos compareciendo y ha sido demoledora su comparecencia ha estado señor díaz pues parece que no se le ha quedado nada ha sido demoledora su comparecencia y desde luego

de remar en este contexto y en esta coyuntura política internacional en tiempos de crisis de remar en la misma dirección y de aumentar los fondos públicos en esa

estaremos de su lado pero desde luego para seguir limpiándole la cara al gobierno no estamos dispuestas a seguir con este juego

con una apartado de un artículo que escribió la coordinadora de ong que por cierto a este gobierno no le gustó nada y lo entiendo que se titula cuando la retórica

y dice es necesario que quienes toman decisiones en despachos sean conscientes de que estas tienen consecuencias para la vida de muchas personas los derechos humanos y la vida digna están en riesgo y no es tiempo de darles la espalda por favor
aplíquense el cuento señorías eskerrik asko urrea anderea

señora gallástegui le voy a dar algunas ideas de dónde se puede sacar el dinero trece millónes de euros del convenio con los colegios de opus que segregan por sexo

firmada por el pnv pse y pp que han hecho que los trabajadores paguen más todavía más y las empresas paguen menos no se escondan ahora

ese éxito recaudatorio se basa en que los trabajadores y las trabajadoras pagan pagamos más eso es lo que viene y podríamos hacer una larga lista de ideas de dónde sacar ese

yo estoy de paso por esta cámara llevo poco estamos todos de paso pero las luchas y los procesos llevan años y

en la primera propuesta de la transacción de los treinta años de la política de cooperación creo que es bastante como para ilustrar la seriedad con que los grupos que hemos firmado esa

tema y lo digo como representante de elkarrekin podemos como ex trabajador de una

de cooperación no soy nuevo en la materia

y miren yo pertenezco a un partido político muy pequeñito

lo hacemos y eso es el ejemplo que queremos que se vaya a el resto de las instituciones

hay una ley en un ayuntamiento puede haber la voluntad o se puede aprobar por los grupos de la cámara como por ejemplo tenía gasteiz y hacía gasteiz pero es que en euskadi ya es una ley aprobada en esta cámara que no se cumple y podrán dar los argumentos que quieran podrán venir con

pero están incumpliendo una ley si quieren poner escusas o quieren poner

el cumplimiento de una ley está encima de la mesa y de eso no ha dicho nada el señor díez y sobre

es muy importante le invito también

le invito a leer mis intervenciones y mis propuestas en materia de cooperación en esta legislatura sobre coherencia de políticas

decimos que tomamos como referencia más allá de nuestro propio programa político el documento de coherencia de políticas que está aprobado por el gobierno

que está metido en un cajón que no se aplica que no se mueve de la agencia vasca de cooperación ese es el problema de ese documento yo también y el señor uría también en alguna intervención ha hablado de ese documento

pesa poco pero vale más que su peso en oro lo que pasa es que no se aplica y hay otros departamentos que hacen

caso omiso y coherencia también es atreverse a decir determinadas opiniones políticas

política ha tenido durante esta legislatura por ejemplo con la situación que teníamos en el puerto de bilbao con la exportación de armas o con la situación en mitad de

se dio en el aeropuerto de bilbao de una carga de armamento destinado a cierto país africano o sobre la opinión del gobierno que no se atreve a rechistar en defensa además del empleo futuro y del desarrollo de esa empresa a una empresa que va

enmarcado también en la estrategia basque country va a construir lo que a simple vista decía el otro día parece un simple tranvía pero que está violando el derecho

ese es el problema que no es una cuestión del peso del dinero que lo que dice la ley es el cero coma siete pero la ley dice de otras muchas cosas y la agencia tiene aprobadas también otros documentos que se llama de coherencia y de eso señor díez no ha dicho absolutamente nada y le invito si no es hoy otros días a trabajar conjuntamente con ese documento y sacar adelante unas iniciativas que en junio

de un día para otro cambió le invito tenemos tiempo todavía eskerrik asko martínez zatón jauna

gracias señora presidenta con su permiso desde el escaño

díez que le felicito por su brillante y clara intervención en relación con esta cuestión

pero también se ha colocado un poco en el lado oscuro es decir yo le decía

al señor martínez y lo ha vuelto a reivindicar en esta segunda intervención para el señor martínez todo está mal lo ha dicho al principio lo ha dicho recordando determinadas ineficiencias o subjetividades en relación con lo que funciona o no funciona pero usted también se ha colocado diciendo que alguien que pasa por aquí

y se preocupa sabrá que la cooperación como le he dicho yo desde el escaño

ha sido ejemplar sigue discurriendo pro un buen camino pero que podemos hacer muchas cosas más

que ha habido más recaudación que hay superávit que puede haber más fondos porque para otras cosas ya hay

política que todos comprendemos para mí no va a ser un elemento de confrontación yo quiero

del lado oscuro y le ruego que usted también lo haga sea un elemento de construcción en relación con esta cuestión y por eso yo quiero reivindicar que el cero coma siete ya se ha aplicado en el ayuntamiento de vitoria

también tengo que reivindicarlo y le pido que usted tome nota muchas gracias

gracias presidenta sí muy brevemente yo para empezar me gustaría certificar una cosa yo creo que hay un acuerdo unánime

de la cooperación al desarrollo en euskadi y creo que a la cooperación y al desarrollo no le viene nada bien

estas situaciones en las que en fin la discusión es un poco elevada en el tono y sobre todo cuando no hay una proactividad para reconocer que desde las posiciones de cada cual hay una apuesta decidida para seguir manteniendo un buque insignia una seña de identidad propia

yo lo que quiero decirle también es que por hacer una mención a los presupuestos del año dos mil diecinueve si yo no me equivoco en la plataforma presupuestaria que eh bildu presentó o planteaba

ni una sola cuestión relativa a cooperación al desarrollo por lo tanto vamos a dejar las cosas en ese sentido yo también quiero decirle otra cosa ustedes dicen que no se ha hecho nada que no se avanza nada que no ha habido ni un paso adelante bueno yo coincidí con usted en la legislatura dos mil doce dos mil dieciséis

llevaba adelante se encargaba de estos asuntos de la presentación de iniciativas en esta materia y reconozco su trabajo su concienciación en relación a la cooperación al desarrollo pero la cooperación al desarrollo no ha nacido con usted quiero decir

se empieza a activar esto y esto me servirá para luego decirle algo al señor

no ha provocado bildu el big bang del reconocimiento

en euskadi con su incorporación a este parlamento en este caso es la primera iniciativa que se presenta en veintidós meses desde que

orientaciones de la que hablamos se han aprobado aquellas propuestas de resolución

hay un reconocimiento expreso a la cooperación vasca y esto no se produce solamente por generación espontánea por lo que se hizo cuatro

ni por ciencia infusa es decir hay una proactividad en el gobierno y yo creo que corresponde

le decía lo de los veintidós meses de inacción porque la última iniciativa de este tipo que yo he visto es una iniciativa de podemos concretamente una moción

exactamente los cuatro puntos de la ahora utilizada enmienda de totalidad que presentó podemos para esta iniciativa yo lo dejo ahí como decía aquel ahí lo dejo pero quiero decir que no vamos a ponernos aquí

tiene que ser conjunto proactivo con el gobierno con la oposición en una materia como esta que como digo tiene que ver mucho con los derechos humanos con la igualdad con la justicia social

yo le adoro a usted señor barrio la verdad es que es usted

y yo sé perfectamente que usted cree en lo que dice

muchas cosas en cooperación al desarrollo sobre todo cuando ha estado en el gobierno ha hecho muchas cosas como por ejemplo

ha llevado una política de aniquilación de recursos

y le voy a poner un ejemplo qué ha pasado en los últimos meses en andalucía por favor señor barrio se han cargado ustedes

como una política pública de la junta de andalucía y no solamente con esa excusa

competencias al estado esto se trata de una apuesta ideológica para suprimir la acción autonómica en andalucía cualquier actividad

tanto autonómico como estatal en este respecto yo no sé si era

pero lo cierto es que hay veces que la política hace unos extraños compañeros de cama

le viene bien yo lo que le pido es que yo estoy de acuerdo con usted coincido con usted le reconozco pero haga usted algo para que su partido siga
por la vía que usted con más sentido común lleva eskerrik asko

señora urrea reír y sonreír no es lo mismo

dice usted que me ha faltado contar un chiste en política yo creo que en este parlamento no faltan formaciones que hacen política de chiste begira

eta gobernuak jardun egin du mira esto es un parlamento y aquí se viene a hablar efectivamente

es muy difícil competir en eso con usted pero también se viene a tomar decisiones y a demostrar responsabilidad y tomando decisiones

una sola decisión que haya tomado su partido que haya beneficiado a la situación de la cooperación al desarrollo en euskadi

donde gobernaban qué han hecho que mejore la cooperación al desarrollo y dice también señora urrea que

ya le he dicho la partida destinada a cooperación al desarrollo

en tres millónes y aumenta en la línea de lo que establece el plan director que usted dice sí conocer pero que parece no conocer porque las previsiones están ahí

señor martínez zatón me habla usted de coherencia de políticas

de la cooperación al desarrollo y creemos que es un pilar de la cooperación al desarrollo en euskadi pero yo le voy a hablar de otro término

un movimiento un círculo no sé de qué es miembro usted que tiene responsabilidades de gobierno en varias comunidades autónomas en el estado me podría decir una sola comunidad autónoma donde se invierta más que en euskadi en cooperación al desarrollo me podría decir una sola ya sé que no tiene turno después pero ya le digo yo no hay ninguna no hay ninguna de que usted ve la paja en el ojo ajeno pero no es capaz de ver la viga en el propio y parece que va de refranes hoy la mañana

leeré gustoso leeré gustoso sus intervenciones no he tenido ocasión de leerlas todas alguna reconozco que sí he hecho pero

señor barrio no sé si es usted aficionado al remo

que nos da buenas noticias porque dice usted que la situación económica en euskadi es tan buena que debemos aumentar que la recaudación es buena porque la situación económica es buena que debemos aumentar

o es que han marcado ustedes tanto un perfil propio que tiene a diferentes perfiles propios incluso dentro de su propio grupo parlamentario

señor barrio señor barrio usted no ha firmado señor barrio usted no ha firmado la propuesta señor barrio

amaitzen joan usted no ha firmado la propuesta transaccional

no la ha firmado pero la ha negociado la ha asumido y parece que la va a votar

y finalmente para terminar señor barrio ha escuchado usted la intervención del señor martínez zatón imagino que le ha oído hablar sobre iberdrola

sobre la caf está usted de acuerdo con eso está usted de acuerdo con eso
no está de acuerdo vale isiltasuna mesedez eso pertenecía a la parte del lado oscuro de la intervención de

una consideración para todos creo que deberían aprovechar lo he dicho en mi primera intervención creo que sus votos hoy todavía son imprescindibles o imprescindibles o necesarios o importantes de cara a configurar una mayoría

aprovéchenlo porque si no lo aprovechan y la partida presupuestaria no aumenta en más de lo que ya aumenta el proyecto de presupuestos creo

cuanto menos la responsabilidad de ir donde ellos y decirles que si esa partida no aumenta en más de lo que aumenta el proyecto de presupuesto es porque ustedes han preferido hacer campaña electoral
que remangarse y ponerse a trabajar eskerrik asko eskerrik asko díez jauna

hau eta orain podría llamar la atención el por qué se hace una iniciativa para proteger permítanme la expresión

las dos preguntas que nos saldrían es por qué protegerlo y por qué quien tiene que protegerlo es el gobierno vasco

cuando la competencia le corresponde al ministerio de medio ambiente en mi intervención breve trataré de responder a estas dos preguntas por qué protegerlo pues evidentemente

tiene un gran valor tiene un gran valor ecológico pero también tiene un valor económico y no tenemos por qué mezclarlos pero la realidad es esta

el medioambiente tiene valor por sí mismo pero además tiene valor para la sociedad en la que se inserta porque aquí nos encontramos con un tramo de costa el de ulia jaizkibel que es un tramo semivirgen donde viven cientos de especies importantes entre ellas delfines y ballenas que acuden a este lugar y porque junto a este trozo de mar hay un trozo de tierra que es la

que ya está protegida y porque la naturaleza no entiende de fronteras

de límites espaciales y lo que está protegido en la tierra no tiene sentido que no

una única continuidad y he dicho que tiene un valor ecológico pero que este valor ecológico a su vez es un valor económico porque

se ha pescado mucho tiempo y se ha pescado bien se han pescado sargos doradas lubinas lenguados salmonetes verdel chicharro chipirones

con mayor productividad el alga agar agar que aunque a algunos no les suene es un alga que se utiliza

pero no hablo de explotar esta zona económicamente sino de protegerla entonces dirán de dónde viene el valor económico pues que cuando protegemos un espacio marino cuando protegemos un espacio marino

múltiples estudios internacionales que demuestran que las áreas no protegidas del entorno

y económico y que se produce un beneficio directo en las zonas circundantes al espacio protegido y aquí tengo que referirme

que está en un declive imparable debido a la sobrepesca tanto la propia como la ajena y por lo tanto proteger las especies

es sembrar hoy para recoger en el futuro porque en torno a ulia jaizkibel tenemos tres puertos getaria

que por sí mismos recogen el cincuenta y siete por ciento de todas las capturas de euskadi y el setenta y cinco por ciento de los ingresos que se

la pesca en nuestro país y sin embargo en estos tres puertos en los últimos treinta y cinco años el declive ha sido de una caída de casi la mitad de la flota

de ahí de ahí la importancia de que el gobierno vasco en lugar de escudarse en la competencia del ministerio de medio ambiente para declarar las reservas marinas adopte de una vez una actitud de liderazgo en esta materia y basándose en el consenso que ya existe en nuestro país se ponga

pero menciono ahora la declaración que hizo la diputación foral de gipuzkoa en dos mil doce el acuerdo en el consejo del gobierno vasco del dos mil trece y sin embargo nada de eso

podemos escudarnos y es verdad que en dos mil trece el ministerio de medio ambiente decidió no hacer caso a la primera solicitud tramitada en su momento por oceana

colegio de biólogos de euskadi pero tenemos que decir también que el gobierno vasco no ha actuado con toda la diligencia que debería en pedir al ministerio que actúe recientemente

el secretario de estado de medio ambiente en funciones el señor hugo morán

que se van a proteger nueve áreas marinas adicionales en toda la costa española de aquí a dos mil veinticuatro pues bien una vez más

va a figurar entre esos espacios y sin embargo debería de estar ahí en dos mil trece el ministerio de medio ambiente argumentó que

y por el colegio de biólogos no era la mejor evidencia científica existente en la materia y por lo tanto se negó a la citada protección

de hoy que ha sido ofrecida a todos los grupos políticos y que cualquier grupo podría haberla presentado lo que se pida sea que el gobierno vasco haga un estudio de continuidad un estudio que asegure que demuestre que hay una continuidad entre el espacio protegido en la tierra

porque ese estudio sin lugar a dudas le pondría mucho más difíciles las cosas al ministerio para denegar esta solicitud y por lo tanto

que haga un estudio que no le costaría nada hacer

años bloqueada y por lo tanto poco más tengo que decir salvo pedir a los grupos que apoyen esta proposición que viene del colegio de biólogos que se ha presentado a todos los grupos y que cualquiera de los grupos podría haber presentado en su nombre lo hemos hecho eh bildu

y elkarrekin podemos pero animamos al resto de grupos a que
lo asuma como propio nada más eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

en dos mil diez el colegio oficial de biólogos y la organización

la zona marítima de ulia jaizkibel debe tener una figura de protección nadie

año siguiente año dos mil trece lakua aprueba varios decretos sobre la red natura dos mil y en el decreto donde en el que se aprueba la creación de sendas zonas de especial conservación en las zonas terrestres

se dice que en un año se debe probar suspensión marítima y también se supone que una vez aprobado esto se traslada la petición a madrid esto es de dos mil trece han avivado antes no han pasado seis años

sí teníamos competencia la ley de patrimonio natural y biodiversidad estatal relativo al treinta y siete punto dos lo deja muy claro se puede y dice

excepto en los casos en que exista continuidad ecológica del ecosistema marino por el espacio natural terrestre objeto de protección

en cuyo caso esas funciones corresponderán a las comunidades autónomas es decir la declaración y la gestión de un espacio marino si tiene continuidad ecológica con otras zonas protegidas

competencia y corresponderán a las comunidades autónomas así que será el caso estaba justificado técnicamente que esto se hiciera así sí estaba justificado en las mismas respuestas que da la dirección de patrimonio natural y biodiversidad

se dice textualmente fue precisamente los trabajos para la designación de estas zonas de especial conservación cuando se puso de manifiesto la conveniencia y necesidad de extender

este tramo del litoral vasco forma un continuo de importancia ecológica geológica y paisajística que se extiende al medio marino existiendo una clara relación interdependiente entre ambos

por otra parte en el ámbito pelágico de esta costa es donde se dan los mayores niveles de biodiversidad marina de euskal herria e incluso del cantábrico oriental

una continuidad el caso es y sigue en los años en dos mil catorce espainiako gobernuak dekretu bitartez

cuando se vuelve a hablar de todo esto y hace dos semanas hemos oído hablar otra vez de tema se habla de la asignación de nuevas zonas tampoco aparece

una serie de organizaciones viendo esto entre las que otra vez vuelve a estar el colegio oficial de biólogos

vuelven a interesarse por el tema y aquí empiezan a hacer preguntas

descubrimos algo muy curioso que en clara contradicción con el consenso político

aquí el gobierno vasco no había pedido la protección de este espacio ante madrid no la había pedido en el año dos mil trece

a partir de aquí el colegio oficial de biólogos empieza a hacer preguntas

va respondiendo que se están haciendo estudios trece de noviembre de dos mil diecisiete se han encargado diversos trabajos

el asunto sin referirse a qué tipo de estudios quién los hace qué plazos tiene etcétera el gobierno está trabajando como muchas veces se ha dicho aquí

y lejos de que las cosas quedarán claras nos dice

que el estudio de oceana que se suponía que era la base científica sobre lo que se había aprobado todo lo anterior no sirve

no hay una documentación escrita les dicen también que por lo visto esto de que se proteja a través de nuestras competencias según el treinta y siete punto dos de la ley de patrimonio natural que eso tiene poco recorrido

ninguna constancia escrita nos dicen que las peticiones que se habían hecho desde el gobierno vasco del año dos mil trece ni siquiera habían sido respondidas

seis años después ni siquiera habían sido respondidas y también queda claro

que darían respuesta a madrid para decir que no tenemos la mejor evidencia científica disponible que tampoco se explica en ningún lado por escrito por qué no y cuál debiera ser

sería necesario un nuevo estudio de continuidad tierra mar

que probablemente haríamos extensiva a la cepa de txingudi es decir que en el año dos mil diecinueve después de todos estos años nos dice

un nuevo estudio que debiera de ser la base científica sobre la que después ir a pelear bien que el ministerio en madrid declarara esa zona como una nueza cepa o bien que se extendiera la protección

y jaizkibel ante esto como no podía ser de otra manera y en colaboración con el colegio oficial de biólogos proponemos

en nuestra proposición de hoy que se hagan esos estudios que se den seis meses al gobierno para que se hagan esos estudios que no se están haciendo

la sorpresa que cuando esto parecía ser lo más lógico del mundo nos encontramos con una enmienda de los partidos que sostienen al gobierno que son simple y llanamente una burla una burla entiendo que al colegio oficial de biólogos a la oposición

que se ha llevado hasta ahora en este tema porque qué dice la enmienda que han traído ustedes dicen que se insta al gobierno vasco a impulsar ante la administración general del estado la toma de acciones necesarias para la protección de la zona sin especificar cuáles son esas acciones

que lo que hay que hacer es un nuevo estudio y sin embargo no se propone que se haga un estudio lo que se propone es en el punto dos que el estudio correspondiente

ecológica y yo digo esto además de ser casi marciana esta propuesta es una dejación de funciones en toda regla es un asunto sobre el que tenemos competencia exclusiva artículo diez estatuto de autonomía punto dieciséis investigación científica y técnica en coordinación con el estado pero no solo eso sino que es una competencia que en ámbito marino está transferida desde mil novecientos ochenta y uno

cómo es posible que este gobierno esté diciendo

el que haga los trabajos cómo es posible que este gobierno no responda a la necesidad que tenemos de ejecutar la posibilidad que tenemos

tanto nuestra como estatal de poder extender la zona de protección

es bajar y decir que más allá de todas las buenas palabras y ninguna buena acción que hay en todo este asunto de protección

qué es lo que realmente les impulsa a no haber hecho ningún trabajo efectivo

confirmado y sigamos en la misma situación y ahora nos diga el gobierno de españa que en este periodo hasta el dos mil veinticuatro

van a proceder a declarar otra serie de zonas nuevas en las que tampoco va a estar recogida

ustedes deben bajar y responder a ver por qué realmente no quieren que se proteja el espacio marítimo de ulia y jaizkibel

gracias presidenta y buenas tardes mi compromiso era intentar ser breve pero verdaderamente va a ser un poco complicado porque hay mucho que decir

puede ser una o muchas dependiendo con los ojos con los que miremos porque ustedes están ocultando información que conocen para interpretar lo que les interesa en función de la votación que pretenden

últimamente estamos empezando a acostumbrarnos en esta tribuna ninguna y sorpresa tampoco porque usted sabía perfectamente qué es lo que íbamos a decir

por lo tanto eso para empezar y segundo ustedes traen aquí un día sí y otro también el respeto a las competencias del pueblo vasco en contra de ese estado español que no nos permite desarrollarnos como pueblo

y son de los vascos y los vascos y para los vascos y cuando no les interesan acusan a quien verdaderamente usted sabe perfectamente que esto es un problema de competencias y de quién puede desarrollarlo y por cierto muy preocupados están ustedes con el tema de ulia jaizkibel desde el año dos mil doce pero estamos en el año dos mil diecinueve

iniciativa y dicho esto como he bajado le voy a explicar porque parece que en aquella comparecencia no se si no escucharon todo o no quisieron entender lo que el ponente en aquel momento quiso explicar tal y como recoge la proposición que ustedes han traído respecto a este asunto que ya fue debatido aquel día

en el que también compareció como usted ha dicho el decano del colegio oficial de biólogos de euskadi allí se expuso

que ahora es el de transición ecológica competente en la materia con el fin de obtener esa mejor protección que no solo les preocupa a ustedes sino que nos preocupa a todos

proponiendo la ampliación de las zonas de las actuales zonas de especial conservación

cuarenta y dos barra dos mil siete de patrimonio natural y de la biodiversidad corresponde a la administración general del estado la declaración y la gestión de los espacios naturales protegidos en el medio marino como usted bien ha dicho

eso ya parece que estamos todos de acuerdo porque es conocer la ley

ver lo que dice y queda claro cuándo es competencia de una comunidad autónoma y cuándo es competencia del estado ante este planteamiento entendemos que si revisan los decretos de designación

no tienen continuidad en el espacio marino y aquí está la explicación del voto en contra del

adicionalmente en conversaciones como usted ha dicho con el ministerio se le traslada al gobierno vasco que el informe presentado por oceana no reúne las condiciones que esperan y que se solicitaría formalmente y por escrito encargar un nuevo informe y en este caso se señala

sino entender que no reúne las condiciones que se pretendían y por eso se solicita otro informe la dirección de patrimonio natural y cambio climático realiza en mayo

que se pronuncie sobre las peticiones cursadas en el dos mil trece trámite que es necesario para poder continuar porque si no

esta vez mediante oficio del director de patrimonio natural y de la directora general de sostenibilidad ecológica de la costa y el mar del propio ministerio se hace lo que se tiene que hacer y se solicita y se está a la espera que ocurrió en mayo que no ocurrió en el dos mil trece

cinco meses han pasado se ha recibido respuesta manteniendo los criterios expuestos por el ministerio

el estudio de continuidad y en estos momentos se está a la espera de la contestación por lo tanto no se puede decir que no se ha avanzado y que no se ha hecho nada

además hay que tener en cuenta que la declaración de nuevos espacios marinos en red natura dos mil por parte de la administración general del estado está aferrado al desarrollo del programa life intermares que coordina

y en la que ha entrado azti como representante de la comunidad autónoma vasca por tanto el gobierno vasco está preocupado y ocupado en este tema

pero no daría continuidad a ulia y jaizkibel por tanto estamos venga a dar vueltas vueltas pero es que usted señor

pero es que podemos darle vueltas y vueltas y vueltas a este tema

pero si no hay una continuidad la competencia la tiene el ministerio y entonces es ahí donde estamos y ya se ha encargado un nuevo estudio respecto al documento citado la protección del espacio marino de ulia y jaizkibel una apuesta científica social e institucional remitido por el colegio oficial de biólogos de euskadi en mayo del diecisiete al gobierno vasco el mismo se recibió con interés por parte del gobierno

pero es el ministerio el que descarta este documento como documento de trabajo volvemos al tema competencial compartiendo o no compartiendo pero volvemos al tema competencial respecto a la afirmación que se dice que yo creo que es subjetiva de que no se aprecia ningún impulso ni un compromiso firme de realizar un estudio de continuidad del medio marino de ulia y jaizkibel por parte de gobierno ni plazo previsto

siempre dentro de lo fijado por la ley y el respeto a las competencias establecidas como no puede ser de otra manera

demostrar la continuidad de ecosistemas tierra mar tiene un recorrido poco probable por lo que la declaración de un espacio marino en red natura dos mil por parte del gobierno vasco en el área jaizkibel y resulta creemos un empeño poco efectivo

suya rápidamente porque usted ha entendido que la nuestra no venía a cuenta y que no respondía

el estudio ha de ser elaborado por el instituto español de oceanografía tal y como le he dicho y como ha sido establecido por el ministerio en contestación ha instado ya al instituto a su realización el estudio realizado por el gobierno vasco previsiblemente no sería tenido en cuenta por el ministerio porque entiende que es él el propio competente

no conduce a ningún sitio el segundo punto que planteaban era un estudio en el plazo de seis meses obviamente si respondiendo al anterior entenderá que este punto no lo vemos y en el punto tercero ustedes hablaban de impulsar decididamente

y nosotros entendemos que la vía de realizar el estudio ya nos ha sido cerrada y que abalan los estudios remitidos también anteriormente por lo tanto

las especies de las que nos ha hablado el señor becerra podemos estar de acuerdo en que hay que hacerlo pero lo que está claro es que la ley está para cumplirla en este tema y en todos y las competencias están para traerlas a esta tribuna y en este tema

y cuando es competencia del estado y podemos seguir dando y dando vueltas

y ya ha encargado un estudio que entiende que responde a las necesidades que ustedes plantean que ustedes creen que lo tiene que hacer el gobierno vasco y que el ministerio entiende
que son ellos los competentes nada más muchas gracias eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak juez anderea zurea da hitza

el mar cantábrico es una de las zonas marinas que menor protección tiene y parece lógico protegerlo ya que estas medidas nunca están de más y no resultan enfrentadas a la actividad económica todo lo contrario al proteger la zona se está protegiendo la vida marina posibilitando la existencia de mayores recursos naturales

según las palabras de los expertos en la materia se daría una conexión de gran importancia entre zonas protegidas

a la protección terrestre ya existente pero demostrar esta continuidad de ecosistemas

limitado vías abiertas con la administración general del estado y desde el departamento de medio ambiente planificación territorial y vivienda se considera que una medida efectiva puede ser la designación por parte de la administración general del estado de la zona jaizkibel ulia como

quedaría dependiendo de la misma administración general del estado con protección algo que consideramos es un gran paso adelante ez naiz gehiago luzatuko

gracias señora presidenta se ha hecho el relato de cuál era el inicio y cómo llegamos hasta dos mil trece dos mil trece es el año

acuerdo y concordia y en el dos mil trece las cosas empiezan a tomar caminos y es cuando la diputación de gipuzkoa manda un informe al ministerio diciendo que reconozcan o metan en su orden o en su decreto de calificación de zonas de especial protección este enclave pero

separar la realidad lo que era un acuerdo empieza a tomar caminos distintos todos reconocen que hay un interés

y necesidad de protección de esta zona y en el documento de dos mil trece de objetivos y medidas

hay una medida la número treinta y cinco creo que es que dice expresamente el gobierno vasco y la administración general del estado cada una en su ámbito

en base a los importantes valores de biodiversidad que posee cuente con una adecuada figura de protección aprobada y declarada en un plazo no superior a un año

esta medida que se pone en este documento bueno pues a pesar de todos estos movimientos y acuerdos que parecían indicar como les decía

hay un parón en dos mil dieciséis el plan estratégico operacional de la eurociudad vasca bayona san sebastián y en sus propuestas también se recoge

por lo tanto este documento también avala el interés

mando aquella alegación en su momento y el gobierno vasco da un paso o echa el freno en la iniciativa la verdad es que sorprenden muchas cosas y uno se pregunta qué dificultades hay para que el departamento comunique o que el departamento no se ponga en contacto con el colegio de biólogos de euskadi que no les cuente

les ha cerrado la puerta seis años con un parón

peticiones de reuniones pendientes que no tienen respuesta por escrito con el ministerio que tienen conversaciones dice el gobierno y es lo que nos decía el director de patrimonio que han estado

hablando pero no hay documentos no hay documentos de que ese informe no es considerado optimo no hay documentos de por qué no se ha incluido

del nuevo proyecto indemares que se puede incluir ulia jaizkibel dentro de todo el corredor parece que

en conversaciones no oficiales no será considerado como mejor evidencia científica

extraoficial pero es que lo que sí nos dijo el director de patrimonio es lo que pone en el primer punto de la iniciativa que la resolución del expedientes puede venir por la designación por parte de la administración general del estado de la zona

su administración en manos de la administración general del estado pero que establecía un régimen de protección para el área es decir lo iban a proteger bien pero no íbamos a ser gestores no iba a ser la comunidad autónoma y luego otra cuestión era que se puede hacer

uniendo ulia jaizkibel por tierra y por mar y entonces sí que

y en eso estamos entonces aquí la iniciativa

exactamente que dice el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que aborde la elaboración de un estudio de continuidad tierra mar del espacio marino situado

especial protección hacia el espacio marino según establece el artículo de

este punto coincide exactamente con lo que dice el director de patrimonio en abril de este año y ustedes van a votar en contra y a mí me gustaría saber por qué porque no entiendo absolutamente nada

la competencia plena de investigación marina que es competencia de esta comunidad autónoma por qué no se cuenta con el colegio oficial de biólogos de euskadi que son gente que viene trabajando muchísimo en esto y que

investigación y por qué el gobierno vasco les excluye de participar en esta investigación

porque tenía que ser una reivindicación del gobierno vasco con el ministerio de incorporar la parte vasca a la investigación y yo me pregunto cuál es el problema para que estén el colegio oficial de biólogos en ese estudio y nuestra competencia aquí dónde queda nos dice el ministerio quién tiene que hacer el estudio y nuestra competencia cómo defiende el gobierno nuestra competencia

entonces por qué solo asumimos el criterio que nos dice el ministerio y no tenemos criterio propio en este tema es que esa es la cuestión por lo tanto

que presentan el colegio de biólogos y que

hay muchas cuestiones que no entendemos y hay una parte bastante oscura y

no están siendo claros ni transparentes y me preocupa que no se reciba al colegio oficial de biólogos de euskadi

porque son los impulsores de que hoy estemos aquí y que el dos mil diez estuviera el acuerdo de esta cámara
por lo tanto señorías creo que el gobierno tiene mucho que hacer aquí y mucho que explicar eskerrik asko

esta proposición no de ley y que se mantenga en su coherencia de considerar el medioambiente como algo

entiendo que no quieran proteger el espacio marino de ulia jaizkibel porque cuando se apoya la destrucción de la zona terrestre de jaizkaibel a través de un centro comercial como zaldunborda pues no sería muy coherente luego querer proteger

pero no entiendo no entiendo la posición del partido socialista en este tema porque en dos mil once en febrero del dos mil once se firmó una transacción

populares vascos socialistas aralar ezker batua donde se decía el parlamento vasco insta al gobierno vasco y al ministerio de medio ambiente a trabajar conjuntamente conjuntamente no se decía que trabaje el ministerio sino a trabajar conjuntamente

entonces estaba el partido socialista en el gobierno vasco y en el ministerio de medio ambiente y hoy vuelve a estar el partido socialista en el gobierno vasco y en el ministerio de medio ambiente y nos encontramos con que el secretario de estado de medio ambiente en funciones

nueve reservas marinas que van desde el mar de alborán el estrecho de gibraltar las chafarinas el canal de mallorca y hasta el cabo tiñoso

que si en dos mil once se firmó un acuerdo de consenso por todos los grupos por lo menos los grupos mantuvieran

que euskadi puede hacer este estudio y que este estudio tiene que ser la base sobre la cual el ministerio declare de una vez por todas la protección

no las palabras la acción del gobierno desacredita completamente todo el discurso que acaban de hacer ustedes y nos vamos a ir otra vez al año dos mil trece

cuando el ministerio en madrid les dice que den una serie que den su opinión acerca de las áreas que había que proteger

las marítimas nuevas lo que dice

es uno pide ampliar por parte del gobierno vasco por parte del gobierno vasco la cepa

que figura en el borrador de orden ministerial o sea que el gobierno vasco sí asume sus competencias en el año dos mil trece

las zonas de protección que son terrestres y tienen una continuidad sí lo hace así que sí se puede usted decía es que las competencias están donde están no sí se puede y el gobierno

pero no hace solo eso hace dos cosas más pide

ulia y la jaizkibel extendiéndolas al medio marino colindante es decir pide

de las zonas de protección terrestres que tienen una continuidad y que van al mar pero es curioso porque a la vez que hace esto que invalida completamente el discurso que ha hecho usted

en la legislatura anterior habla de ampliar el gobierno vasco y no el ministerio con lo cual sí invalida lo que usted ha dicho hace una distinción que en algunos casos habla

o la cabecera del cañón de capbreton y la cabecera del cañón de capbreton es la que está siendo ahora considera para ser aprobada en dos mil veinticuatro y sin embargo dice que estudiar y valorar la propuesta

con lo cual evidentemente ante la petición del gobierno vasco que amplié la zona de capbreton por ejemplo y que estudie o que valore otras propuestas que hay

pues coge lo que le interesa y lo que no le interesa lo deja y lo deja aparte

sí hay continuidad y no me vale que me diga señora rojo que no hay solución o sea

que se va a proteger están muy lejos de la costa en la práctica

con el discurso que han hecho es que no piensan proteger

de ulia y jaizkibel eso es lo que nos están diciendo en realidad y ustedes tendrán que explicar por qué

dos y solo dos una corresponde por competencias al ministerio a madrid y es la creación de una nueva cepa marítima en la que la creación la designación y la gestión

la continuidad de la conservación de las zonas terrestres sí tenemos competencias como creo que no tengo que leerlo otra vez como dice el artículo treinta y siete punto dos de la ley de patrimonio natural y biodiversidad con lo cual con lo cual

lo que entiendo y lo que estamos pidiendo que haga el gobierno vasco es que asuma las competencias propias y explore esa vía

evidentemente tiene que hacer un estudio que es lo que se está pidiendo aquí tiene que hacer ese estudio porque para una nueva cepa o para estudiar los cañones de capbreton

hará los estudios que estime oportunos pero sí queremos esa ampliación que es posible por competencias insisto una vez más

que además para eso tenemos la competencia atribuida y azti debiera hacer ese trabajo y no dejarlo en manos de terceros yo lo voy a dejar aquí

estas acciones tomar una vía u otra o las dos que las dos se podían tomar

cuando se amplió la zona o cuando se intentó ampliar la zona marítima del espacio de urdaibai el ministerio lo convirtió en una cepa nueva de cabo de ogoño toda esa zona de urdaibai muy bien no pasa nada

y después venga el gobierno de madrid y nos ponga una cepa

quedaría el entorno protegido y ustedes están renunciando a la primera y todavía no han explicado por qué porque por cuestión de competencias no es y de todos modos y ya que no ha salido

lo dijo el señor tellería en una comisión mala cosa es intentar utilizar los espacios de protección

para ir en contra de una infraestructura determinada pues yo les digo lo mismo es al contrario mala cosa es intentar jugar con las figuras de protección para ir a favor de una infraestructura y todos sabemos y aunque no ha salido hasta ahora en el debate aquí hay cuatro palabras mágicas

y se llama puerto exterior de pasajes puerto exterior de pasajes

es lo que está detrás de toda esta negativa hacer las cosas como hay que hacerlas

que por cierto esta portavoz ha hablado una vez no dos veces no tres veces no y diez repasemos la hemeroteca de cómo empiezan los discursos y cómo acaban los discursos porque en fin ustedes se dedican aquí a hacer lecciones de todo y entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se dice no utilicemos las competencias a favor o en contra de infraestructuras no vaya a ser que

hayamos intentado utilizar las competencias que tenemos en el país vasco para proteger determinadas cosas señor otero que todos tenemos historia y hemos hablado de unas infraestructuras otras veces

que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las cosas y ver si realmente tenemos todo tan limpito en nuestra casa para empezar a salpicar a la casa de los demás

protección de la zona sí respeto a las competencias también y

que cuando vienen determinados colectivos al parlamento muchas veces algunos grupos políticos nos hacemos o no

y a los colectivos hay que decirles la verdad la y no crear frustración y no decir que se puede hacer lo que no se puede hacer porque usted otros no pero usted se conoce las leyes de medio ambiente y lo que pasa en el ministerio mejor que yo

usted se conoce porque en más de una ocasión me ha mandado mire este documento

por tanto usted lo conoce perfectamente entonces digamos a la gente la verdad digámosle que ese informe que hicieron

entonces no creemos frustraciones no digamos siempre a los colectivos lo que quieren oír digámosle la verdad y usted sabe perfectamente que eso es un tema competencial y señora lópez de ocariz

porque claro a veces se mira más a madrid o menos a madrid en función de quien gobierne y alguna moción de censura marcó mucho esto en este parlamento y por terminar señor becerra

ha dicho la verdad ha nombrado una serie de zonas a proteger y claro que

pero ya lo he explicado por qué no ya ha pedido un nuevo informe para seguir tratando

en detrimento de otros es que ha dicho las cosas como son con la ley y las competencias en la mano y la iniciativa de dos mil once decía trabajar conjuntamente claro que sí

se ha reunido no una vez ni dos ni tres está trabajando conjuntamente

pero siempre teniendo en cuenta de quienes son las competencias porque hay veces que hay que acudir a madrid para reclamar esto lo tengo que decidir yo pero hay otras veces que las cosas no son así

y en este caso hemos vuelto a hacer una bola de todo esto cuando únicamente el tema es que queremos proteger pero las competencias están donde tienen que estar esperemos

que se ha pedido por parte del ministerio y veremos cómo entre todos podemos proteger la zona pero respecto a las competencias sí pero siempre

ez dakit entzuten da bueno no iba a intervenir pero la verdad es que como está claro que la mejor defensa un buen ataque

y oh sorpresa ahora resulta que el partido popular tiene una trayectoria mucho mayor que la nuestra que la del partido nacionalista vasco en temas medioambientales tiene una mayor credibilidad cuándo han estado en madrid qué ha pasado con este tema lo he dicho y lo repito tema de competencias

podemos seguir en la rotonda pero dónde está la competencia

no se puede y el gobierno vasco ha llegado hasta donde podía y seguirá en ese camino pero la competencia no está aquí y bueno pues esa es la verdad esa es la interpretación la única interpretación que cabe y desde luego

se verá hasta qué punto le damos importancia al medioambiente a su defensa y a su respeto sí o no eskerrik asko

ante esta situación quiere mostrar su rechazo a la violencia su exigencia a las autoridades de observación

su solidaridad con quienes apuestan por políticas públicas de igualdad las abismales diferencias y que mejoren la calidad de vida

por la negociación y acuerdo amplio entre las partes para resolver esta preocupante situación y por la solidaridad con quienes más surgen

al importante y numerosa comunidad de vascos y vascas que allí residen